eskatzen duten segurtasun publikoko eraginkortasun eta efizientzia parametroak desde el pasado catorce de septiembre del dos mil quince en la que la abogacía del estado recurrió la ope de la veinticinco promoción de la ertzaintza hemos pasado muchos meses como el profeta isaías clamando en el desierto

además del incumplimiento de la legalidad estatutaria y de los acuerdos bilaterales adoptados en la junta de seguridad

han sido numerosas las reclamaciones públicas y privadas del lehendakari del gobierno vasco y de los representantes del partido nacionalista vasco aquí

reclamando algo básico el respeto al autogobierno la retirada de los recursos y la aplicación de los acuerdos de la junta de seguridad

el acceso en condiciones de igualdad a las bases de la europol e interpol

contra el terrorismo y el crimen organizado han sido reiteradas las preguntas interpelaciones urgentes mociones proposiciones no de ley etcétera que el partido nacionalista vasco ha presentado en el congreso y en el senado reclamando respeto

siempre la misma no no en las votaciones no en las negociaciones no al diálogo

las exigencias de las instituciones vascas han sido continuamente desoídas se aducía que eran imposibles de aceptar incluso se llegaba a afirmar que vulneraban la legalidad y resulta que de la noche a la mañana lo que por ejemplo el veinticinco de octubre del dos mil quince era del todo imposible para el partido popular

el pasado treinta y uno de marzo en el consejo de ministros y ayer mismo para mayor abundamiento el señor rajoy iba incluso más allá

qué ha pasado qué ha convencido al señor rajoy de la conveniencia de reconocer el carácter de policía integral de la ertzaintza

al que se refiere mateo en su evangelio pero hay una realidad probada durante todos estos últimos años

son capaces de mover las voluntades más enrocadas cuando se trata de que el gobierno español de turno no tiene mayoría absoluta y esto

pero es así por todo ello señora consejera

una vez superado los obstáculos jurídicos y políticos que venía manteniendo el estado le pregunto qué pasos va a dar el departamento de seguridad para avanzar

su pregunta señor iturrate una vez más quiero recordar que en el caso de la ertzaintza no estamos hablando de una oferta pública de empleo para la generación o para cubrir nuevas plazas

de lo que se trata es de mantener el número de agentes que fue pactado en la junta de seguridad para responder adecuadamente a las competencias que otorga el estatuto de

como policía integral de euskadi en este sentido con el real decreto aprobado en el consejo de ministros el pasado viernes volvemos a la normalidad normalidad que se vio alterada desde el mismo momento en que el gobierno de españa interpuso el primer recurso contra la promoción veinticuatro

solo en los tres primeros meses de este año han sido ya noventa y ocho personas las que se han jubilado y ciento veinticinco más han solicitado

tienen previsto jubilarse este mismo año la edad media de la plantilla ronda ya los cuarenta y ocho años es por tanto inevitable asumir esta realidad planificar una salida responsable una salida ordenada consciente también de que son datos que pueden sufrir variaciones a día de hoy la previsión con la que trabajamos es que a lo largo de esta legislatura se jubilen

estamos por debajo muy por debajo del número de agentes acordado en la junta de seguridad actualmente siete mil seiscientos cuarenta incluidos en este ratio

de la promoción veinticinco que ahora mismo se encuentran en prácticas aspirantes que de acuerdo con el acuerdo alcanzado ahora podrán incorporarse como funcionarios y funcionarias de carrera a la ertzaintza este mismo año en el mes de septiembre cuando lo hagan

y en el mejor de los casos este periodo será de más de treinta y ocho meses para los que están inscritos e inscritas en la promoción en la convocatoria de la promoción número veintiséis y esto no tenía sentido no tenía ningún sentido no tenía sentido poner vetos que impidieran a corto plazo contar con el número de

asumidas y ofrecer los servicios que demanda la sociedad vasca tampoco tenía sentido romper

principio de bilateralidad que debe regir los acuerdos de la junta de seguridad

del gobierno de españa hay que recuperar el tiempo perdido tras la primera prueba de selección

de mayo la promoción veintiséis podrá iniciar su formación a principios de octubre atendiendo a las necesidades reales de

de la propia ertzaintza y atendiendo a las necesidades y a las capacidades de formación de la academia

incluso convocar una nueva promoción promoción que no será de menos de trescientos personas y está previsto que accedan a su periodo de formación en la academia

segundo semestre de dos mil dieciocho y este ritmo es el que tendremos que mantener a lo largo de los próximos años en la planificación de renovación generacional de la ertzaintza

señora kortajarena el objetivo principal de las medidas que anuncié en la

fueron la mejora de la gestión de la renta de garantía de ingresos y la modernización de lanbide

he solicitado y así voy a comparecer el próximo lunes en la comisión de servicios sociales las medidas no están destinadas únicamente al control del fraude

ágil y eficaz para la ciudadanía y para quienes trabajan día a día en la atención a las personas los objetivos de estas primeras medidas

y nuevas más que vamos a ir presentando se sitúan en tres ámbitos el primero el interno

por otra parte y en segundo lugar dirigido a las personas destinatarias de la prestación agilizando las resoluciones y en tercer lugar y en relación con la ciudadanía en general

y sus efectos positivos en la actual sociedad estas medidas van mucho más allá de un simple control del fraude ya que su objetivo principal

y la renta de garantía de ingresos las medidas que estamos poniendo en marcha están dirigidas a optimizar el trabajo en las oficinas a promover una mayor coordinación con otras administraciones agilizar las tramitaciones y a mejorar las condiciones de trabajo del personal según su cuestionamiento señora kortajarena parece que las mejoras del servicio solo persiguen los casos de fraude y no es verdad enumerar todas ellas más de diez exactamente y la mayoría se refieren a mejoras del servicio

para este gobierno como así lo ha demostrado desde su implementación es necesaria es una herramienta necesaria para garantizar la cohesión social para evitar la pobreza y promover el acceso al empleo evitando situaciones de cronificación en el paro decía usted por qué no se ha informado

en los procesos internos de lanbide y lo que tiene que ser el debate serio y sosegado que hagamos en esta cámara en relación a la ley de garantía de ingresos

es necesaria para que en la sociedad vasca no surjan desequilibrios sociales

de esta prestación especialmente en situaciones de crisis económica y también

hay quien ha banalizado que este plan de mejora centrándolo

cuando ella no deja de ser simplemente la aplicación de las nuevas tecnologías para una mejora de la atención

hoy en día las personas nos identificamos mediante huella dactilar dentro de las organizaciones y las empresas modernas y lanbide lo es

las medidas anunciadas únicamente tienen como objetivo la mejora del servicio son las adecuadas y están enmarcadas en la modernización de lanbide no busque segundas

las propuestas que el señor maroto hizo no son las que nosotros hemos planteado nosotros hemos planteado mejoras en la gestión para que todos los ciudadanos que se relacionen con lanbide

a la hora de gestionar las prestaciones y las relaciones que tiene con esta organización

otro motivo es la mejora de la gestión de los ciudadanos en relación a lo que es lanbide y lo que es su objeto de trabajo eskerrik asko artolazabal andrea

es inaceptable que continuamente se esté hablando de estas personas y poniéndolas bajo sospecha este parlamento le hizo a usted un mandato muy claro el quince de diciembre le corresponde a usted

un pacto social de amplio consenso pero para eso tiene usted que escuchar

escuchar a la calle escuchar a los sindicatos escuchar a los agentes sociales escuchar a las personas que en este momento están en huelga de hambre

a entidades como cáritas que se lo están diciendo muy claro que ellos no tragan le voy a decir señora artolazabal también que debe usted parar y reparar y retomar el camino correcto en este ámbito que no es otro que la defensa de los derechos de las personas y colectivos más vulnerables porque señora artolozabal por si no le ha quedado claro le voy a decir

tampoco tragamos estamos hablando de dignidad estamos hablando de dignidad

señora kortajarena desde luego yo no le voy a admitir

ni de criminalizar a ningún colectivo con las medidas que hemos puesto en marcha yo lo comentaré en la próxima comisión pero desde luego esas acusaciones son falsas y este gobierno no se lo va a permitir hemos sido los líderes

eskerrik asko presidente egun on sailburu en el mes de enero la asociación de madres y padres

que había detectado prácticas y situaciones que podrían no respetar la legislación en materia de matriculación en varios colegios concertados de euskadi en concreto

entre otros anunciaban en sus páginas webs periodos de prescripción o matriculación no oficiales en los que ofrecían a las familias la posibilidad de rellenar cuestionarios con sus datos

el decreto por el que se regula la admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados del país vasco dispone que el procedimiento de admisión del alumnado en cada etapa educativa será común para todos los centros objetos de este decreto así como los procedimientos de admisión tiene que ser escrupulosamente respetados por todos ellos

que pueda implicar reserva de plaza con anterioridad no cumple el reglamento establecido carecerá de efectos por tanto como parece evidente

no oficial parece que no está contemplada en la normativa y si el calendario es común y debe ser

no deberían de tener cabida en dicho calendario ni tampoco se adecúan como dice el decreto al escrupuloso respeto del mismo que deben observar las escuelas en cuestión en una respuesta del departamento se especifica que si estas prácticas se daban el departamento y por tanto le pregunto si estas prácticas contravienen la legalidad y vulneran los derechos de las niñas niños y sus familias y si el departamento de educación ha iniciado en el presente
curso escolar algún expediente y en caso afirmativo cuáles han sido eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko

eskerrik asko como decía esas prácticas que yo creo sí que se conocen

prescripciones no oficiales que hay en varios centros escolares no creo que merezca la pena sacar todos los ejemplos lo que estamos diciendo es cierto que hay una aplicación

como son centros concertados financiados también con fondos públicos qué sentido tiene que haya centros concertados todos ellos concertados

que hagan estas listas antes de la matriculación oficial qué sentido tiene si el departamento tiene alguna idea o alguna opinión acerca de ese tema y si esto puedo vulnerar

pública porque de ese no respeto de los problemas que tenemos en las matriculación que no solo son estos se derivan mucho de los problemas que luego tenemos en educación vasca como pueden ser y lo volvemos a decir como

en muchos casos en el acceso y la segregación por eso pensamos y en este momento aprovecho también para proponer al departamento de educación una vez más que estas prácticas no se deberían de producir que se deben de

y que también hay que seguir proponiendo mejoras en este sentido como por ejemplo única oficina de matriculación que garantice la igualdad de oportunidades que a todas las familias les llegue la información por igual porque no es lo mismo una oficina de información que una oficina de matriculación y además una oficina que sea transparente por el bien de la educación

en la que se denunciaba a otros centros que estaban realizando prácticas similares la inspección de educación analizó la publicidad de los centros y comprobó que era similar

recientemente ha firmado usted la orden que da inicio al proceso de relación del

cómo va a desarrollarse el derecho subjetivo a acceso a una vivienda digna que estableció la ley de vivienda aprobada por este mismo parlamento en junio de dos mil quince lege hau

también con los socialistas vascos en el gobierno cuando la entonces consejera de justicia idoia mendia puso en marcha en colaboración con otros departamentos

al igual que hoy la oficina de mediación hipotecaria una oficina antidesahucios que a la vez que pionera fue ejemplo y espejo para otros gobiernos locales y autonómicos

ochenta agentes públicos sociales y privados implicados en materia de vivienda que permitió orientar las líneas estratégicas y ámbitos de actuación en esta materia

que impulsara y facilitara la aplicación de la política de vivienda dentro de unos acuerdos consensuados para satisfacer el derecho constitucional

la puesta en marcha de políticas que fomentaran el alquiler de viviendas pero que sin embargo

puso en marcha otro proyecto de participación ciudadana sobre el anteproyecto de la ley de vivienda

ciudadanos que aportaron casi doscientos propuestas de mejora de las cuales se incorporaron al texto el cuarenta y cuatro por ciento de las mismas hoy

estamos en el momento clave de iniciar la redacción del derecho del decreto regulador

de dicha ley el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna un derecho equiparable a otros derechos sociales ya consolidados como el derecho a la educación o a la sanidad

de la capacidad que tuvimos el pasado mes para acordar la necesidad de iniciar ese camino hacia una sociedad más igual con más oportunidades y con más derechos para nuestros ciudadanos y ciudadanas y que además por expreso deseo del propio departamento

y respaldado por la unanimidad de esta cámara contará una vez más con un proceso participativo plural abierto a toda la ciudadanía y agentes sociales

del decreto regulador del derecho subjetivo a acceso a la vivienda le pregunto qué contenidos va a desarrollar en el proyecto del decreto del derecho subjetivo a la vivienda

el pasado veinte de marzo firmé la orden para iniciar el proceso de redacción del decreto

el derecho a la vivienda en este decreto se desarrollarán reglamentariamente las siguientes cuestiones objeto y modos de satisfacción del derecho a la vivienda requisitos que han de cumplir quienes lo soliciten

el procedimiento para el reconocimiento del derecho subjetivo la prestación económica de vivienda su naturaleza carácter y destino

y extinción de las prestaciones y finalmente el reintegro de las prestaciones indebidas mi departamento

las líneas de actuación de la legislatura ha asumido el compromiso de desarrollar

que finalice el presente año no es una tarea fácil ni sencilla porque estamos hablando del núcleo esencial de la ley de vivienda pero vamos a abordarla

a hacerlo le anticipo también que nuestro compromiso

ni en requisitos ni en cuantías de los derechos reconocidos actualmente

diversas normativas que tratan esta cuestión primero por convicción y porque este es el espíritu de la ley de vivienda que los socialistas impulsamos en el gobierno del lehendakari patxi lópez y después en esta cámara en la pasada legislatura

en este parlamento además queremos que el proceso de elaboración de este decreto sea lo más abierto y participativo posible

a otras administraciones o a dar audiencia a asociaciones que representan a colectivos de personas afectadas directamente estoy hablando de participación abierta

por eso desde el departamento de vivienda vamos a impulsar una práctica ya habitual en nosotros

sobre el proyecto de decreto un proceso que estará abierto

y ciudadanía en general y que se desarrollará de forma paralela al procedimiento administrativo y como usted

hace cinco años como consejero de vivienda recogí

otorgó a nuestro departamento en reconocimiento del proceso participativo que llevamos a cabo para la elaboración del proyecto de ley de vivienda y otros procesos participativos

que efectivamente tuvieron un importante éxito y colaboración ciudadana que permitió que se incorporaran al proyecto de ley y también a las políticas de vivienda muchas aportaciones de colectivos de agentes y ciudadanos en general que tuvieran abierto el camino

nuestra herramienta básica será la nueva web de participación ciudadana del observatorio vasco de vivienda

y que queremos que sea un instrumento no solo de información y opinión sino también de participación activa y real de la ciudadanía en las políticas públicas
de vivienda muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

consejeros señorías yo le voy a hablar también de la rgi nosotros tenemos un sistema

muy desarrollado tiene una dotación de recursos y una capacidad de atención que seguramente muy pocos se pueden permitir en europa y en ese sentido creo que es la expresión

a muchas personas que tienen ingresos bajos bien porque tienen pensiones bajas o personas que todavía no han podido insertarse laboralmente en euskadi seguramente porque no tienen el arraigo suficiente y también da atención a personas que no tienen otra manera

quería decir esto en primer lugar me parece que es razonable que tengamos un sistema de ayudas maduro y desarrollado y yo lo celebro en segundo lugar también le quería

que la mejor política social es el empleo y que el objetivo en la legislatura tiene que ser seguir impulsando el crecimiento económico

ese crecimiento económico en términos sociales y en términos sociales es creación de empleo términos sociales también es que aquellos colectivos más desfavorecidos con mayor dificultad de inserción puedan también encontrar un acceso al trabajo y que por tanto nuestra ilusión

en el presupuesto a lo largo de los años y eso será indicativo del éxito que tienen nuestras políticas o que no tienen nuestras políticas yo

que en ese capítulo y mientras se mantenga esa visión habrá suficiente apoyo en la cámara para poder impulsarlo he escuchado a la consejera y vi su anuncio también

que se han anunciado y que se van a explicar en la cámara la próxima

es verdad que hace falta un mayor control del fraude porque la percepción del fraude desprestigia

y esa es una inquietud social realmente existente y que es transversal y que ocurre en personas de cualquier ideología y sentimiento identitario no ocurre solamente a las personas que son del pp aunque se haya hecho con más vehemencia eco de esto que está en la calle el partido popular pero yo le quiero hablar hoy de otra cosa en relación con esta cuestión

saben ustedes que cuando llegaron a la diputación de gipuzkoa el gobierno del pnv

era una ayuda complementaria que había puesto en marcha aquella diputación que desvirtuaba los requisitos que nosotros hemos planteado para el sistema de la rgi puesto que rebajaba

ese requisito de años de empadronamiento cuya admisión es

a juicio de la diputación de gipuzkoa producía un efecto

el caso es que la quitaron pues bien el gobierno de su partido en el ayuntamiento de vitoria ahora ha puesto una ayuda que es muy similar

el sistema de la rgi creo que tiene que haber una cierta homogeneidad entre territorios y una cierta igualdad de derechos y la petición que le quiero hacer a usted y a la consejera es que abordar la nueva reforma se regule efectivamente las ayudas que también prestan el resto de instituciones y que por tanto vayamos a un sistema homogéneo que no desvirtúe

una inquietud o un rechazo social a un sistema de ayudas que entre todos esta legislatura hemos de volver a prestigiar muchas gracias eskerrik asko

señor alonso yo creo que como usted bien ha dicho la consejera de empleo y políticas sociales ha sido ya suficientemente explícita en la respuesta a la segunda pregunta sustanciada

en el punto del orden del día de hoy yo insistiré en que

respondiendo a un compromiso adquirido tanto en el acuerdo de coalición entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi como también con el programa de gobierno

y que fue presentado también ante este parlamento y está respaldado por el acuerdo presupuestario me interesa también insistir en algunas cosas que creo que han de quedar claras el presupuesto dota la renta de garantía de ingresos

responde también el planteamiento de reforma estructural a la proposición no de ley que el quince de diciembre de aprobó en esta cámara aprobada por todos los grupos y que la consejera y el gobierno vasco asumimos

dicha reforma estructural el próximo quince de mayo el presupuesto que aprobaremos el martes dota la renta de garantía de ingresos con más de cuatrocientos millónes de euros esta cifra duplica la cuantía que se destinaba en dos mil ocho estamos comprometidos con el modelo vasco de políticas sociales que es un referente en el estado y del que todos deberíamos sentirnos orgullosos y agradezco señor alonso su criterio con respecto

la reflexión sobre la reforma estructural de la renta de garantía de ingresos por lo que usted me pregunta también pivota sobre estos pilares propuesta integral sostenible y eficaz que garantice la atención a las personas más necesitadas

como usted también planteaba la cronificación en la marginación de las personas perceptoras porque efectivamente la apuesta tiene que ser por más empleo y de mayor calidad y gestionar de forma más eficaz las ayudas para evitar el fraude también en relación con la última petición que usted planteaba nosotros vamos a proponer la reforma estructural

con realismo con resolución porque nuestro objetivo es alcanzar el máximo consenso posible en esta cámara y extenderlo también al resto

muchas gracias señora presidenta tengo ocho segundos reiterar la petición

haremos la propuesta de reforma integral aquí en el parlamento en la búsqueda del mayor consenso posible en el parlamento y consenso que sea extensible también

insisto en que la reflexión estamos procediendo ya a dicha reflexión con el ámbito primero de revisar

segundo con la mejora de la coordinación con la tesorería de la seguridad social tercero con la mayor personalización de lanbide para incentivar la inclusión laboral cuarto con la creación de un grupo específico anti fraude y coordinación con las policías locales y quinto con la implantación del sistema de reconocimiento basado en la huella digital sin

incluidas por lo tanto mejora en la gestión insisto en que no partimos de cero que el sistema de garantía de ingresos y de inclusión social nació hace casi treinta años que es fruto de un amplio consenso que ha sido pionero en el estado que simboliza la solidaridad del pueblo vasco

protegerlo también insistiendo ante el conjunto de la administración vasca y vamos a actualizarlo vamos a trabajar por la excelencia y así el gobierno vasco se ha

el objetivo de conseguir un certificado de calidad en la tramitación de la renta de ingresos esta es la mejor muestra de nuestro compromiso con la mejora permanente del servicio que tenemos que ofrecer

mahaiburu andrea la idea de construir una planta de depuración de residuos animales parte de una problema real que se dio en el valle de carranza que se da en el valle de carranza aunque no solo se da

del territorio existe un problema con el purín y con el número de cabezas de ganado concentradas pero lo que en un inicio

derivó desde el minuto uno en una forma de obtener dinero público al margen de si el resultado se iba consiguiendo o no al margen de si se iba haciendo la planta o no desde el primer impulso al proyecto todo estuvo orientado a un control absoluto por parte de quienes se beneficiarían de estas subvenciones recibidas así que debido a esta actuación además de perderse en beneficio privado una cantidad importante de dinero público se comprometió para siempre la posibilidad de la construcción de la planta así como de dar una solución

con la imprescindible colaboración del por aquel entonces director de investigación agropecuaria del gobierno vasco

instituciones del gobierno del reino de españa cuatro millónes de euros de la diputación foral de bizkaia dos millónes de euros y del gobierno vasco cuatro

de los cuales se recibieron alrededor de diez apropiándose de la mayor parte de ese dinero sin haber apenas iniciado la construcción de la planta que está en las mismas condiciones que entonces y para obtener ese dinero se falsearon datos que se incorporaron a expedientes oficiales consiguiendo así una financiación absolutamente desproporcionada

y la que finalmente se realizó falsearon desde el inicio el coste del proyecto las fechas de realización del mismo su finalización y con estos datos más que dudosos

una y otra vez hemos denunciado en esta cámara y fuera también

a personas que supuestamente han desviado dinero público pero lejos de exigir responsabilidades ustedes han movido más bien poco diría yo incluso podríamos decir que prácticamente nada porque deberían ejercer todas las acciones judiciales posibles en los juzgados y lo que nosotros entendemos que ha prevalecido

como poco mal gestionado el dinero público creo que creemos que no han hecho todo lo que podía el daño económico desde luego ya está hecho pocas veces se ve una trama igual a esta para conseguir tantos millónes de euros nada más que además de tres administraciones diferentes

contra los responsables que no pueden quedar amparados ante este fraude con implicación directa de cargos públicos e incluso de funcionarios

donde han participado diferentes organismos y administraciones informes del tribunal vasco de cuentas públicas

implicación activa además de la abogacía del estado del ministerio fiscal pero la pregunta es qué ha hecho el gobierno vasco en todos estos años cierto

abierto entendemos que solo faltaba que no lo hicieran y hace muy poco otro escrito para adherirse a la causa penal abierta paralelamente en el juzgado de balmaseda

al que habían defendido hasta su imputación dos escritos eso es todo en definitiva hechos más que graves posiblemente incluso delictivos ante los que cualquiera administración hubiera actuado utilizando todas las vías que son muchas como lo han hecho y nos lo han demostrado el ayuntamiento el gobierno de españa zergatik ez da egon eusko jaurlaritza epaiketan interes publikoa gardentasuna eta herritar guztiok galdutako

hori da galdera mientras hemos visto cómo ha ido cambiando el proceder de las distintas administraciones el ayuntamiento como perjudicado con su actitud en los diferentes procedimientos judiciales abiertos y sus iniciativas hay que reconocérselo han logrado que el proceso esté ahora en el momento en el que está

para poder decir que estamos ante un presunto fraude por lo menos a la vista de los datos la abogacía del estado incluso se adhirió a la causa penal en los juzgados de balmaseda

desaparecido en el juicio hasta última hora es más que preocupante

se dirige por un director un cargo político que es quién decide el proyecto qué proyecto se hace qué subvenciones solicita a quién se conceden es además quien hace el seguimiento al convenio firmado cuando a la vez es partícipe del consejo de administración de la empresa

y luego además es delegado consejero de karrantzako minda la empresa que recibe las subvenciones hasta pocos días antes de declararse el concurso de acreedores es un cúmulo de despropósitos así vistos y en la línea en que suceden

no es ni siquiera un proyecto que haya salido mal es un proyecto sin más objetivo que recoger todas las subvenciones posibles y dirigirlas a ciertas empresas ciertas empresas que todos y todas sabemos

estaban dirigidas me van a disculpar pero esto no pinta nada bien no pintaba tampoco nada bien entonces pero ahora cada vez peor

no podía salir bien incluso si hubiera habido una buena voluntad desde el minuto uno que yo pongo en duda también la pregunta es si para este gobierno es normal si han funcionado los principios mínimos de transparencia en que todo el rato están en esta tribuna del que todo el rato se habla y si su actitud pasiva y renuncia a exigir responsabilidades bueno pues responde al compromiso que el gobierno tiene con la ciudadanía

en favor del gobierno entendemos que deberían acometer una profunda revisión de los mecanismos para la concesión y control de subvenciones

debería ser una prioridad además de este gobierno primero recuperar el dinero desaparecido y desde luego

sabemos lo sabemos que la solución de esos purines no pasa por grandes plantas ni grandes proyectos faraónicos

y desde luego apoyando el sector primario que ahí yo creo que hemos fallado en este caso ya no cuela lo de la personación en el procedimiento concursal no pueden estirarlo más es lo único que han hecho y desde luego no es lo único que han podido hacer

porque no han investigado no han participado en el juicio no han estado ahí interrogando a los testigos

no participar pero desde fuera parece como si hubieran acordado no hacerlo para evitar males mayores yo creo que en todo caso las cosas empeoran hay que decir que están a tiempo estamos a tiempo de recurrir la sentencia puede recurrir la sentencia del juzgado de lo mercantil y pueden demostrarnos que estamos equivocadas

a su respuesta cuando diga que respetan la sentencia ha salido hace una semana han declarado

en este despropósito nada ha ocurrido por casualidad y eso lo sabían antes de empezar solicitamos que el gobierno vasco interponga el recurso porque está a tiempo porque está en días hábiles ahora para hacerlo pero no solo para defender el interés público y recuperar el dinero desaparecido sino por todo lo que dice la sentencia en relación al gobierno vasco y que utiliza la jueza para exonerar además la responsabilidad a los responsables de este gran fiasco

da por probadas multitud de facturas falsas presentadas y que la administración encima no pusiera ninguna objeción

apunta una descoordinación dentro del propio gobierno por lo incomprensible de no exigir el reintegro completo de la subvención famosa ya ikerketa dos mil seis que se presentó en blanca y finaliza diciendo que no

resoluciones administrativas en esta jurisdicción esto es muy grave porque esta sentencia no hace más que certificar que el gobierno incumplió la normativa en la concesión en el control en el pago

por cierto certifica cada uno de los incumplimientos que enumeró el tribunal vasco de cuentas públicas en su contundente informe bien explicado además acabo

y si ustedes van a seguir de forma

y ya ahí se ponía claramente de manifiesto que la actuación del gobierno desde el año dos mil trece había sido

en la tramitación de todos los procedimientos administrativos previstos en la ley para la reintegración de las cantidades satisfechas y no justificadas en relación con este asunto todas

encaminadas al reintegro de esas sumas de esas ayudas concedidas satisfechas y no justificadas hoy la administración es titular de un crédito por valor de tres coma dos millónes de euros parte del cual estuvo en la masa concursal del procedimiento al que se refiere usted uno cinco millón aproximadamente de euros el resto no estaba

no lo estaba porque cuando arrancó el procedimiento concursal todavía la administración estaba llevando a cabo tramitando estos procedimientos de reintegro de las sumas satisfechas y no justificadas y por tanto no reunían las condiciones

la presencia y la incorporación en la masa del concurso de esos créditos usted cita al tribunal de cuentas efectivamente el tribunal de cuentas ha llevado a cabo

hay un informe de fiscalización del tribunal vasco de cuentas públicas de mayo del año dos mil doce crítico evidentemente crítico se hizo amplia referencia a

comparecencia a la que me refiero y por tanto no voy a insistir ahora en argumentos que ya se aportaron ahí que constan ya en los diarios de sesiones de la cámara

de euskadi remitió el expediente al tribunal de cuentas del reino

por parte de la jurisdicción por la sección de enjuiciamiento de una responsabilidad contable por alcance

que no en aquel momento todavía no se daban las

todavía no se constataba la existencia de un perjuicio económico real y efectivo no había un procedimiento

los procedimientos de reintegro y por tanto ese daño efectivo ese quebranto económico necesario e imprescindible para que pueda identificarse la existencia de una responsabilidad

está pendiente o está abierto por lo menos hasta este punto con un procedimiento claro y explícito del tribunal de cuentas del reino queda la vía penal usted dice

ha hecho lo que tiene que hacer está personada en el procedimiento penal exactamente igual que el resto de los autores y personada como perjudicada

actuó intervino en representación de un funcionario del gobierno que como tal funcionario tiene derecho a la asistencia letrada del gobierno cuando se trata de actuaciones que son objeto de enjuiciamiento en las que esa persona ha actuado en su condición de funcionario pero en una actuación había sido citado a declarar en concepción de testigo y en concepción de testigo en calidad de testigo

luego se puso de manifiesto por parte del juez correspondiente de la juez de instrucción

que pasaba de ser testigo a ser investigado y a partir de ese momento ya la defensa del gobierno se quebró pero el gobierno está personado como perjudicado en ese procedimiento

en diligencias previas y por supuesto está como titular de un crédito por tres coma dos millónes de euros

y que va a llevar todas las actuaciones judiciales necesarias para que en el supuesto de que evidentemente el

y la condena conlleve una responsabilidad civil la responsabilidad civil incluya esos tres coma dos millónes de euros que deben al gobierno y que pueden suponer perjuicio económico a las arcas públicas del gobierno pero hasta el final

eskerrik asko berriro me alegro me alegro escucharle la verdad que

de todas maneras tengo la sensación y creo que no es una sensación absolutamente mía solo

necesitaban urgentemente dar respuesta a un problema a un problema que lo he dicho antes también está pasando ahora y que sirvió no solamente para no dar solución a esos problemas sino para crear una trama de empresas de intereses que incluso es difícil hasta entenderlo

confiar confiar en el gobierno tanto en el procedimiento concursal que

ya están ahí yo confío en que den todos los pasos y porque además los elementos que se juzgan tanto en uno como en otro o que se han juzgado son distintos entonces yo tengo confianza

la verdad pediría cautela cautela en los nuevos proyectos que tenemos encima de la mesa ahora con las mismas caras y

en la misma dirección cautela ante grandes megaproyectos que salen aquí para dar

también quería decir lo he apuntado aquí como rápido trece millónes de euros prácticamente diez con diez millónes de euros si

se hubiese dado solución a todos los purines del territorio y ya acabo nos queda la esperanza de que esto no se vuelva a repetir yo confío en que esto no se vuelva a repetir porque esto es un fiasco ha sido

decepción porque la intención podría haber sido buena había dinero encima de la mesa y desde luego no

de todo el dinero público que recibe para proteger

y para no dar respuesta a lo que tenemos que dar utilicémoslo bien gestionemos y hagamos una coordinación entre todos que yo creo que unos o las dos partes pueden

yo comparto con usted el respeto máximo por el sector primario me consta que usted está directamente vinculada con él

procedo también del sector primario no del mundo agrícola pero sí del mundo pesquero

y mire en fin para acreditarse en el mundo de la pesca siempre se ha dicho que hay que tener un pariente cercano que pagó tributo a la mar con alguna vida no mi abuelo murió en la mar

primario por tanto el máximo respeto por lo que a mí respecta y me consta también que por parte de la consejera responsable del área

más allá del peso que pueda tener el pib de euskadi en una sociedad ya muy industrializada desde el punto de vista

pues hay que operar con cautela yo comparto con usted que la cautela es absolutamente imprescindible ha de guiar los pasos de la administración pública cuando afronta no solamente los grandes proyectos también los pequeños proyectos pero inmediatamente después

que pueden tener elementos en común con este que tenemos entre manos me ha dado la sensación de que como decía la abuela de un amigo mío

está usted jugando un poco con la confusión y ya como todo es para la ropa vamos a hablar del hijo y jabón como si fueran lo mismo no el hilo y el jabón son para la ropa pero son cosas completamente distintas los residuos tienen sus cosas y el sector primario pues tiene su estamos hablando de hechos

las decisiones que se tomaron entonces las condiciones en las que se adoptaron

más sólidos claro es muy fácil evaluar desde la altura en la que estamos ahora

prefiero asumir responsabilidad en relación con lo que tenemos ahora usted ha planteado una interpelación en relación con lo que el gobierno va a hacer para rescatar ese dinero

de la que dio la consejera amplia cuenta en aquella comparecencia a la que me he referido por supuesto vamos a emprender una acción firme en el terreno penal del que le mantendremos informada si desea usted en defensa

que ya están reflejados en ese personamiento cuando el juzgado de primera instancia y de instrucción de balmaseda número uno nos ofreció acciones algo que ocurre

es la primera vez que nos ofrece acciones y hay que esperar a que actúe el juez antes de

nosotros nos personamos inmediatamente y en el personamiento hicimos valer nuestro interés económico e inmediatamente después en virtud de ese conflicto de intereses al que antes le he hecho referencia declinamos la representación en juicio de un funcionario que

pero como concurría un conflicto de intereses renunciamos a esa defensa en juicio

un abogado particular a partir de ahí estamos en una fase todavía preliminar en diligencias previas está por ver qué

la juez en este terreno pero le puedo asegurar que el gobierno va a estar firma en la defensa del eventual quebranto económico que haya podido

exigiremos hasta el último céntimo de euro del que pueda acreditarse en el seno del procedimiento que una actuación tipificada y condenada

haya producido un perjuicio económico a las arcas públicas del gobierno

resolver esta discrepancia alcanzar un acuerdo es una cuestión prioritaria para el gobierno vasco

para todas las instituciones políticas del país y para la sociedad vasca en su conjunto eta hor kokatzen dugu legebiltzarraren papera legebiltzarrak bizkaia gipuzkoa eta arabako

para sustraer el modelo de concierto económico y cupo de la legítima disputa partidaria y electoral pero dicho eso

con el español es nuestra responsabilidad así se establece en el estatuto de autonomía

y no tenga duda una vez alcanzado el acuerdo se ratificará en la comisión mixta donde participan también otras instituciones como son las tres diputaciones

y precisamente creo en el papel de los grupos de este parlamento que cuentan también con representación en el congreso los acuerdos que se alcancen deben contar con su respaldo

mire señor lehendakari la realidad es que el señor erkoreka esta semana ha dicho ya

pero la voluntad de un gobierno del pp que no ha querido ni oír hablar del cupo mientras tenía mayoría absoluta es decir una voluntad interesada

ni con el respeto al autogobierno vasco nada de nada un posible acuerdo que siento decírselo no parece fruto de esa mesa de equipos técnicos de ambos gobiernos sino de las negociaciones entre dos partidos pp y pnv para aprobar los presupuestos de un gobierno del partido popular y un posible acuerdo que este parlamento desconoce

usted decía sí que acumulamos más de diez años de desacuerdo pero en el ámbito propio de negociación de las comisiones de trabajo de los dos gobiernos y no de otro ámbito de negociación

tanto en el ámbito de la liquidación de los cupos pendientes de dos mil siete como en las bases para la metodología de señalamiento del cupo dos mil diecisiete dos mil veintiuno

de políticas activas de empleo y fondo social europeo en la negociación de los dos gobiernos

la suficiente información y nuestro empeño es alcanzar un acuerdo normalizar las relaciones con el gobierno español y poder regularizar financieramente las discrepancias existentes para consolidar la vía de relación bilateral efectiva

entre las dos instituciones gobierno español gobierno vasco suscrito después posteriormente

ayer en esta cámara en este mismo atril el señor

el diario de sesiones se maravillará ante la clarividencia del partido popular que en contra de la opinión de todo el mundo mantenía la única tesis verdadera yo creo que no se maravillará este hipotético observador del futuro de que el partido popular tuviera la razón sino que se maravillará

de que el partido popular tuviera representación en este parlamento vasco porque el partido popular está cuesta abajo el partido popular está cada vez más marginado

por necesidad y también por convicción nuestra disposición ha sido abierta a todos los partidos hemos presentado la misma propuesta sin vetos ni condiciones propias

de realismo y responsabilidad tan simple como eso señor casanova el acuerdo alcanzado es positivo y lo digo así es positivo

y el partido popular porque va más allá de los veintinueve millónes euskadi cuenta por primera vez con un presupuesto superior

este presupuesto permite incrementar los recursos para los servicios esenciales de salud educación y protección sociales estas tres áreas recibieron en dos mil trece

seis mil quinientos cuarenta y uno el año pasado y seis mil setecientos cuarenta y ocho este año son los datos oficiales es jugar a la pequeña

y no hay ningún recorte señor casanova garantía de servicios esenciales no recortes más inversión crecimiento empleo este es el alcance total del acuerdo presupuestario para el ejercicio dos mil diecisiete

ahora sin ánimo de abrir ningún debate en fin quería rechazar naturalmente los insultos que el señor casanova vierte sobre mi grupo al que califica de ser un grupo de extrema derecha bueno no voy a reproducir los insultos que usted ha dicho aquí porque sinceramente no insulta quien

de hacerlo pero sí quería decir nada más que el señor casanova seguramente sufre un ataque grave de celos presupuestarios y que si nosotros hemos podido llegar

a un acuerdo con el gobierno es porque nos hemos encontrado

ha sido porque nos hemos encontrado en la centralidad y ese es un lugar que a usted le queda todavía muy lejos

tejeria anderea imagino que si la fuente de espalación de neutrones estuviera en manos de eta esta sala estaría llena ahora mismo pero

señora uriarte debido a una decisión cuestionable de la mesa

pero sirva también porque concierne a todo el gobierno el consorcio para la construcción equipamiento y explotación de la sede española de la fuente

más conocido como ess bilbao es un proyecto que nació fruto del acuerdo firmado

este convenio fijaba en ciento ochenta millónes de euros el coste inicial del proyecto de los cuales setenta y cinco millónes eran financiados por el gobierno central y los ciento cinco restantes por el gobierno vasco a través de aportaciones regulares comprometidas hasta dos mil veintidós

reducidas a la mitad y por razones diversas en los seis años transcurridos ya desde la firma de aquel convenio el proyecto ha ido sufriendo diversas vicisitudes

entre todas ellas el cese de la financiación por parte de las dos instituciones firmantes así el gobierno central cerró el grifo en dos mil doce como parte del drástico recorte que ese año el señor rajoy brindó a la ciencia y a la investigación en españa para satisfacer a la troika y a la banca

desde entonces hasta ahora a la falta de financiación se han sumado desencuentros políticos profesionales y personales decisiones desacertadas incomunicación interinstitucional y otros muchos factores que han puesto el proyecto al borde del abismo a la plantilla a un paso del desempleo y a la ciencia vasca y española ante un panorama

el pasado lunes durante la sesión de debate y votación de las enmiendas parciales al presupuesto del gobierno

al igual que estamos exigiendo a otros proyectos que impulsa el gobierno y la verdad es que me pareció un buen hilo argumental para esta interpelación así que me detendré en esta cuestión

ambiciosos que europa tiene entre manos tanto en lo que se refiere a su alcance científico como al impacto económico

es decir noventa y tres millónes de los cuáles setenta y tres millónes son en especie

una vez que euskadi perdió en su día la carrera por ser la sede principal del proyecto en favor de suecia el hecho de que sea en jundiz y en zamudio donde se desarrollen los citados equipos y trabajos implica no solo un volumen de negocio razonable si no la posibilidad de que las empresas vascas se sumen y participen en un proyecto tecnológico de máximo nivel teniendo en cuenta que a día de hoy

que cincuenta y seis millónes de euros se quedan directamente aquí pero además durante los cuarenta años de vida del proyecto ess bilbao seguirá recibiendo pedidos

esta misma semana se ha conocido que el gobierno central ha presupuestado dieciocho millónes de euros para ess bilbao en este año dos mil diecisiete y otros treinta millónes más hasta dos mil veinte es una buena noticia que se haya desbloqueado la financiación por parte de madrid pero ahora la pelota está en el tejado del gobierno vasco

debate de presupuestos que está pendiente de concluir desde elkarrekin hemos planteado una enmienda parcial para destinar cinco millónes de euros al proyecto pero los grupos que apoyan al gobierno la han rechazado esto significa que en este ejercicio de dos mil diecisiete ess bilbao contará con dos de presupuesto por parte del gobierno vasco uno del departamento de educación otro del departamento de desarrollo económico no obstante nuestra enmienda volverá a presentarse este próximo martes ante el pleno

qué piensan hacer para asegurar la financiación del proyecto si la rechazan de nuevo pero por otra parte más allá de la financiación que sin duda es crucial es preciso rehacer los canales de comunicación entre el gobierno vasco y el gobierno central

los que se han roto entre la universidad del país vasco y ess bilbao

el primero que exista un apoyo político decidido y sin fisuras

pero también que el gobierno vasco confirme su apuesta por mantener la sede en euskadi cerrando de una vez

el segundo factor fundamental es que exista una financiación

poder cumplir tanto con los hitos del proyecto como con los compromisos internacionales adquiridos sin retrasos ni estrecheces financieras y en tercer lugar es necesario un proyecto científico claro y realista que posibilite la colaboración entre la upv y el consorcio ess bilbao

y consensuadas y que tenga en cuenta tanto las capacidades del tejido empresarial local como los condicionantes específicos propios de un proyecto internacional como ess bilbao

se pudiera recuperar el proyecto inicial de este gobierno vasco de que euskadi pudiera contar con una fuente compacta de neutrones tal y como se planteaba en sus inicios y desde luego esta sería sin duda una buena noticia para la industria vasca ahora bien lo que es seguro en cualquier caso es que

ese otro proyecto también resulta inviable y en segundo lugar me centraré en impacto social me gustaría hacer referencia a ello porque

para mi grupo elkarrekin podemos las personas son sin duda la mayor preocupación

sesenta y cinco profesionales de alta cualificación y valía estas personas forman parte de eso que las instituciones suelen llamar pomposamente el capital humano de nuestro país

en lugares muy diversos pero que han decidido establecer aquí en euskadi su lugar de trabajo y residencia si el consorcio cesara su actividad ahora

en encontrar trabajo en otros lugares y países en el corto plazo

este año el gobierno va a dedicar uno coma cuatro millónes de euros a la tracción de investigadores internacionales a través de ikerbasque y casi otro tanto ha presupuestado la diputación de bizkaia por su parte

al tiempo que escatima los fondos necesarios para que se quede el talento que ya está aquí muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

muchas gracias señora presidenta buenos días señoras y señores consejeros

en esta interpelación yo me alegro coincidir con el señor becerra en relación con la preocupación que hoy nos ocupa

anunciar en relación con la vinculación en relación con unos compromisos que va a hacer suyos el gobierno vasco

bilbao y en ese sentido sí que es cierto que también nosotros queremos plantear esa preocupación y es que además

del consejo de la fuente europea de neutrones por espalación reunidos en bilbao expresaron su

será pronto miembro de pleno derecho del consorcio de este proyecto el estado español participa en este proyecto por medio del ess bilbao como todos sabemos un centro participado por partes iguales por los gobiernos central y vasco que nació para optar a ser sede de la fuente europea de neutrones

becerra la ciudad sueca de lund donde se construye actualmente

orientarse para trabajar en proyectos para la fuente de lund pero bueno en teoría

para el desarrollo industrial para la innovación para la investigación acogió bilbao

estaban representados quince países miembros y observadores en la reunión se habló sobre los últimos avances en el desarrollo del proyecto que se encuentra un veinticinco por ciento de la ejecución y cuya inversión total ya se ha recordado será

expresó su convencimiento de que el estado español que ha sido desde el inicio un socio vuelvo a decir clave en el proyecto lo decía él será muy pronto miembro de pleno derecho del ess destacó que además que hace un par de semanas dijo en relación con diciembre

de la instalación lo que ratifica el compromiso de españa con el proyecto por su parte además el nuevo director general del consorcio señaló que el proyecto necesita de la experiencia y de las capacidades del ess bilbao

y en la necesidad de vinculación del gobierno en el que usted se integra señora uriarte

para que tanto las instituciones españolas como las empresas puedan tomar parte de ese proceso

urgente necesidad de pasar a ser miembro de pleno derecho de la eric de la ess para poder llevar a cabo

se señaló que el estado español ha sido el primer país en hacer entrega de un trabajo en especie doscientos bloques de hormigón para el blindaje etcétera el ess bilbao también se ha recordado en la interpelación anterior

personas de primer nivel técnico y científico es un consorcio público en el que participa al cincuenta por ciento la administración general del estado

por ello el gobierno central y vasco acordaron otorgar un presupuesto

dos mil diez a dos mil veinticinco de ciento setenta y ocho millónes de euros también se ha recordado qué pasa señora

qué pasa qué análisis puede hacer porque ya hemos visto algunas comunicaciones que ha tenido usted y la señora tapia con la empresa con el comité de empresa y algunos pero la situación

de euros del gobierno de españa y dos euros del gobierno vasco

dos euros no sé una bolsita de neutrones genéricos además tendría que ser ya que está con

nos tiene que explicar y nos tiene que dar buenas noticias señora uriarte en relación con este tema o es la bilateralidad

dos euros el gobierno vasco no sé yo creo que la cosa es muy seria nos la tiene que responder nos estamos jugando mucho nos estamos jugando sobretodo esa pertenencia al programa

nos pide cosas para primavera de dos mil dieciocho y la cuestión pasa por los compromisos presupuestarios el gobierno de españa

se ha comprometido además ya lo vimos la disposición porque leímos una carta que la secretaria de estado de investigación desarrollo e innovación había mandado

al comité de empresa diciendo que el cumplimiento de los compromisos como no puede ser de otra manera una prioridad

mediante la modificación del convenio para asegurar la financiación hasta dos mil veinticinco plazo de construcción de la fuente

este ministerio ha propuesto que en los presupuestos generales del estado para el dos mil diecisiete que están en preparación

en dos mil diecisiete un crédito público que le permita cumplir los compromisos adquiridos en ese sentido

que nos consta también que en los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco se va a incluir

dos euros hemos visto desde luego llamadas de

y de las necesidades del propio ess bilbao en relación con esa situación y nosotros también

queremos saber qué pasa señora uriarte nos resulta incomprensible que

que se desatienda de esta manera es posible que usted nos dé alguna clave de vinculación económica de asunción del ess bilbao como

yo creo que es el elemento clave y además ese factor interesante importantísimo

del gobierno de españa la colaboración del gobierno vasco y la integración en un proyecto

proyectos punteros en el mundo en relación con esta capacidad y esta investigación científica y además que todos sabemos porque ya se nos ha asegurado todos sabemos que no hay que tener peligros ni riesgos en que los retornos y la capacidad de vinculación

se vinculan a esas posibilidades y además otros miedos

el hecho de poner en orden de poner en la actuación y en el concierto toda esa cuestión que

que desde luego yo lo sé por la otra parte del consorcio que poder colaborar con instituciones como la universidad del país vasco no pero no paralelamente sino confluir en la colaboración es decir

algo grave ha fallado en relación con los compromisos del gobierno vasco no sé qué nos podrá decir pero sobre todo

de recelos o de agravios lo que sí que tiene que haber señora consejera es un compromiso de futuro con una infraestructura científica tecnológica clave para
el futuro de euskadi también eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

legebiltzar presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok en respuesta a las dos interpelaciones planteadas

en relación al proyecto de ess bilbao me van a permitir que empiece por hacer un resumen del desarrollo del citado proyecto

han tenido influencia en haber llegado al punto en el que nos encontramos el proyecto ess bilbao surge a alrededor del proyecto de fuente de espalación europea

como centro de investigación especializado en el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas ambas finalidades de ess bilbao se financian mediante las aportaciones de la administración general del estado y del gobierno vasco a tal fin la administración general del estado

el convenio de colaboración relativo a la construcción equipamiento y explotación de la sede española de la fuente europea de neutrones por espalacion

que con dicho objeto es gestionado por el consorcio para la construcción equipamiento y explotación de la sede española de ess ess bilbao debo insistir en que el consorcio se constituyó con dos objetivos fundamentales

y por otra con el objetivo de construir un centro de investigación independiente especializado en el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas hau da

es decir tal y como he dicho atender a la parte de la aportación de recursos y paquetes y por otro lado en paralelo

en el ámbito de la aceleración de partículas principalmente en el entorno local en el que se ubica el centro una vez reorientado y redefinido el proyecto

reducir la aportación de españa a la fuente europea hasta el cinco por ciento actual

ha continuado su evolución contando en la actualidad con elementos sustanciales que eran desconocidos a finales de dos mil diez y que culminan con la constitución a mediados de dos mil quince de un consorcio europeo de infraestructura de investigación de los previstos en el reglamento setecientos veintitrés barra dos mil nueve de consejo europeo de veinticinco de junio european research infrastructure consortium european spallation

en el que finalmente se ha acordado con los restantes socios internacionales la participación del estado español en consecuencia la definitiva participación de españa

para seguir avanzando en la colaboración y en la construcción de la fuente de espalación europea con garantías

y esta es la única garantía por ello el gobierno vasco ha trabajado incansablemente todo este tiempo para que se lleve a cabo la adscripción

debo añadir que existen dos categorías de socios del proyecto eric ess

observador y socio fundador tal y como he dicho antes españa está facultada en exclusividad

ya que la adhesión puede ser únicamente realizada por los estados miembros actualmente españa forma parte del consorcio como socio observador

subrayar que los socios observadores tienen nula capacidad de asegurar la disponibilidad de paquetes de trabajo de interés científico pues bien tal y como he dicho antes uno de los objetivos fundamentales es precisamente ese el valor científico así

desde principios de dos mil quince ambas administraciones hemos estado inmersas en un proceso de negociación sobre el futuro de la colaboración en relación al consorcio ess bilbao en el marco

aprobaron en el consejo rector de ess bilbao de fecha de doce de junio de dos mil quince un acuerdo por el que se comprometieron a detallar su colaboración hasta dos mil veinticinco

esta necesidad de acordar una nueva adenda está relacionada con que en el acuerdo de dos mil diez

tanto en lo económico como en el ámbito científico tecnológico en consecuencia estamos ante un escenario que debe adaptarse a las nuevas circunstancias y atender a los nuevos retos que establece el eric la decisión fue fruto de un consenso y una negociación entre

en los que se compartió que la única forma de contar con paquetes de trabajo asignados a ess bilbao con ciertas garantías para el periodo dos mil dieciséis dos mil veinticinco era que españa suscribiera el acuerdo de incorporación al eric ess en calidad de socio fundador así

fórmula bajo la cual se podrían justificar los compromisos económicos tan relevantes que habrían de adquirirse en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco hasta dos mil veinticinco

eskatu du gobernu honek baina gaurdaino ez da halakorik gertatu además desde la fecha del acuerdo del consejo rector de junio dos mil quince

entre ellos la publicación en el diario oficial de la unión europea de la decisión de ejecución

en la que se indica que el reino de españa ha dado a conocer su decisión de participar inicialmente en el eric fuente de espalación europea

no en calidad de socio fundador sin que mediara comunicación previa con esta administración poco después el treinta y uno de agosto de dos mil quince

el ess como un consorcio de infraestructura de investigación europea

el ministerio de economía y competitividad anunció en el congreso de los diputados que el gobierno español preveía ser miembro fundador del consorcio europeo

lo antes posible y en cualquier caso antes de septiembre de dos mil dieciséis lamentablemente esta afirmación no se ha visto cumplida hasta la fecha más adelante

se produjo la aprobación de los presupuestos generales del estado con la omisión de las partidas económicas asignadas a ess bilbao para el periodo dos mil dieciséis dos mil veinticinco

máximo órgano que rige el acuerdo entre las dos administraciones en dicho consejo rector además se acordó no realizar nuevas aportaciones económicas a ess bilbao ya que había disponibilidad suficiente para el desarrollo del proyecto mientras se negociaba la entrada en el eric laburtuz administrazio honek

bazkide sortzaile gisa como he dicho en junio de dos mil quince se acordó en el consejo rector que la administración general del estado suscribiría el european research infraestructure consortium european spallation

sin embargo españa no pudo suscribir el acuerdo para formar parte en el consorcio en agosto del dos mil quince y tras esa fecha ha solicitado dos prórrogas para su adhesión al eric ess en calidad de socio fundador en fecha de siete de febrero de dos mil diecisiete en marzo de dos mil diecisiete finalmente se remitió a esta administración la confirmación de la concesión de la prórroga a españa así como las condiciones para la adhesión dichas condiciones se centran en la necesidad de definir un calendario

en la necesidad de cumplimiento de los objetivos adquiridos en los paquetes críticos así como la concesión de una prórroga para la formalización de dicha adhesión

señora uriarte aunque es cierto que el señor

en parte en nuestra exposición sobre la necesidad de la financiación del ess bilbao creo que habrá podido ver claramente que

yo he dejado claro que la financiación no es lo único que se necesita

evidentemente y de hecho mi intervención no ha sido para designar en este asunto que existan malos y buenos sino para dejar en evidencia que existe un problema existe un problema que requiere

usted se ha referido exclusivamente a la necesidad de que el gobierno de españa solicite

que es necesaria evidentemente es necesaria es imprescindible el señor barrio no la ha mencionado pero yo sí lo he hecho pero también es cierto que usted sabe

y que necesita un compromiso y un calendario de financiación por parte del gobierno vasco que no se ha producido que no se ha producido y que evidentemente no es el único problema pero que está ahí y

ya existe la financiación por parte del gobierno del estado qué financiación va a tener por parte del gobierno vasco evidentemente dos euros no es suficiente y

entonces evidentemente no estamos solamente ante un problema en exclusiva de financiación pero sí estamos ante un problema grave de financiación que condiciona todo el proyecto pero más allá

y que toda aquella intención de generar un valor científico y tecnológico

y ess bilbao y también esos puentes están rotos a día de hoy y entiendo que no es de recibo y no vamos aquí a entrar en mayores profundidades que también en ese asunto se establezca una política de buenos y malos la universidad es la buena el

entonces lo que sí le pediría es que en su última réplica nos aclarase

el martes que viene vamos a mantener nuestra enmienda por valor de cinco millónes de euros que ni de lejos es lo que necesita ess bilbao pero

una primera aproximación a un compromiso más serio por parte del gobierno vasco y nos gustaría saber

no hay por parte del gobierno vasco una alternativa de financiación más allá de un presupuesto de dos euros que como comprenderá después del anuncio del gobierno del estado

creíble desde el punto de vista del compromiso político del gobierno para asegurar la viabilidad de este proyecto muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta también brevemente gracias señora consejera por

pero señora uriarte nos ha dicho lo que ya sabíamos

algunas circunstancias algunas situaciones de hecho pero

a lo que nosotros le pedíamos nos ha demostrado lo más preocupante de todo

con un proyecto tan importante es decir muchos de ustedes al lehendakari a la consejera responsable de

a usted misma hemos visto en muchos sitios llenándoseles la boca

euskadi en la investigación en el desarrollo tecnológico y aquí no aquí

en relación con este tema con cuestiones meramente administrativas y de falta de vinculación

porque eso nos hace ver que hay un desaliento en el gobierno vasco en relación con estas cuestiones en vez de una vinculación si se ven reticencias o recelos en la otra parte pues hay que ponerse por delante en vez de por detrás y agazaparse señora uriarte no señor esto no puede ser a nosotros nos ha dicho que en el momento en el que el gobierno vasco

a la situación a este momento de falta de actuación

en relación con sus compromisos en relación con los calendarios todo está arreglado

o sea no se puede quedar todo empantanado señora uriarte no se puede estar se está trabajando para la incorporación al eric el hecho de que se pidan prórrogas

con aspectos que tienen que ver con la innovación con la tecnología ha sufrido pero se ha mantenido lo suficiente para que ahora lo podamos retomar y lo ha retomado el gobierno de españa

incansablemente en relación con este tema y usted ha dicho que están trabajando incansablemente no es verdad

reflejo está en los presupuestos que es el elemento fundamental de la voluntad política de un gobierno

lehendakari cuando habla de la importancia de los presupuestos los acuerdos tiene razón es decir mira y además es verdad las labores administrativas

tema entre estados entre gobiernos centrales en relación con esas historias pero ustedes tendrían que están secundando de verdad con entusiasmo con

lamentable de este momento en vez de habernos respondido a estas interpelaciones con no se preocupen ustedes

porque vamos a cumplir los compromisos y porque nos vamos a vincular de verdad al proyecto y porque tenemos previsto que este año vamos a hacer esto y que el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte

en relación con este tema de tal de tal y cual como ya lo ha hecho el gobierno de españa pero usted no lo ha hecho y se lo exigimos y se lo vamos a exigir y se lo vamos a exigir y seguramente que la cámara se lo exigirá

no sé se están quedando en esos recelos y la verdad claro que españa quiere ser socio fundador

a pesar de las vicisitudes que se han pasado pero está esa llama viva que ha podido a pesar de las

con la continuidad del proyecto y hacerlo sostenible hacerlo viable hacer que se cumplan sus trabajos sus encargos y que se pueda seguir trabajando pero por parte del gobierno de españa no por parte del gobierno vasco

dos euros en los presupuestos de la comunidad autónoma vasca uno de su departamento y otro del departamento de la señora tapia eso está mal

háblenos de compromisos económicos ahora mismo y háblenos de calendario de aquí a dos mil veinticinco muchas gracias

con respecto al cumplimiento de los objetivos fundamentales del consorcio de ess bilbao tal y como dijo recientemente en esta sede parlamentaria la consejera tapia

bestalde helburu horren parte da gure enpresen gaitze teknologikoan sakontzean ere tenemos que tener claro que nuestro objetivo en relación

estos son los motivos que realmente nos preocupan y nos indican que hay un incumplimiento de los objetivos fundamentales de esta colaboración

a pesar de que haya personal investigador y grupos con mucho bagaje y conocimiento sobre este ámbito y que por lo tanto deberían estar trabajando con ess bilbao por otro lado no ha habido un incremento en la investigación básica en el ámbito de la neutrónica en euskadi como consecuencia de las inversiones realizadas más allá del contexto del centro así la producción científica es escasa en relación a otros centros de investigación locales por ejemplo ess bilbao ha colaborado en la realización de cuatro tesis doctorales en todo este periodo de las cuales tres se han realizado en la upv ehu una en el año dos mil once y dos en el dos mil catorce

y el resto en universidades de fuera de la comunidad autónoma del país vasco

en lo que a la capacitación tecnológica de las empresas locales se refiere

de que también se vaya avanzando en esta dirección así la dirección de ess bilbao debiera de haber trabajado más en la aportación de equipos y en general en la relación con nuestro tejido empresarial

tal y como la consejera tapia afirmó en este hemiciclo si como gobierno vasco tenemos que hacer una aportación importante a ess bilbao desde luego será y así estaba escrito desde el inicio para que también nuestras empresas tengan capacidades y vayan creciendo en la aportación de equipos y en su trabajo para ess bilbao

actualmente ess bilbao está volcada en la realización de una labor más vinculada con la ingeniería y la producción de las contribuciones

relacionada con la neutrónica en euskadi como consecuencia de las inversiones realizadas en ess bilbao

ni que los grupos de investigación vayan a tener un desarrollo en este ámbito que pueda permanecer más allá del periodo de construcción de la fuente de espalación europea

en lo que se refiere a la noticia aparecida en los medios de comunicación y que han planteado en su intervención sobre la aportación por parte del estado de dieciocho millónes de euros para ess bilbao en dos mil diecisiete

una autorización para que ess bilbao pueda endeudarse en dieciocho millónes es decir no ha habilitado una partida económica para ess bilbao por esa cantidad sino que dicha autorización

en ess bilbao que deberá ser reintegrada por ess bilbao además dicho endeudamiento debiera ser acordado y aprobado en el consejo rector de ess bilbao lo cual en todo caso sería un acuerdo de endeudamiento de ambas administraciones no solo de la administración general del estado para su información hasta la fecha no ha sido acordada ni aprobada esta decisión en el consejo rector por otro lado

aparecen unas cantidades para los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte

es decir no suponen créditos comprometidos para ello debiera darse un acto administrativo que corrobora dicho compromiso firme de aportación y ese acto no se ha dado por cierto

una serie de cantidades para ess bilbao tanto en el departamento de la señora tapia como mi departamento que también indica nuestra voluntad y estaban también el año pasado

para la suscripción del eric con el plurianual pero siempre con dos premisas

la primera en relación con los investigadores de la universidad y la segunda en relación a sus empresas locales

no vienen de hoy evidentemente que vienen de atrás y que estamos trabajando para solucionarlos seguimos trabajando con el estado para mejorar la situación

pero también es cierto que las más importantes las de alto nivel tecnológico esas son las que se han escapado

sino porque haya habido una gestión que se puede hacer de otra forma en resumen los últimos años del proyecto ess bilbao se han caracterizado por su aportación casi en exclusividad

ess bilbao ha aportado un valor tecnológico muy relativo a la comunidad autónoma

como en relación con la industria de la ciencia local sin embargo no hay que olvidar que este valor tecnológico

así pues nuestro objetivo fundamental se centra en exigir que estos objetivos se aborden adecuadamente cuestión que llevamos reclamando de manera reiterada

mil novecientos noventa y ocho tiene como objetivos por un lado establecer un marco normativo para desarrollar las políticas

crea los instrumentos que coordinan las políticas y las actuaciones administrativas para conseguir los objetivos de desarrollo rural que se fijan en la ley landaberri

la cooperación y coordinación necesarias para la aplicación de la ley de desarrollo rural en las funciones de landaberri están

sus modificaciones los decretos que lo desarrollan información previa a su aprobación y por otro lado informar con carácter previo y preceptivo los proyectos de ley los proyectos de decreto del gobierno vasco los programas y los planes

a las zonas rurales bien por referirse de manera específica a las actividades económicas o por referirse a los servicios y actividades culturales de las mismas o porque condicionan a futuro las actividades y servicios o pudieran

las condiciones para cumplir los objetivos de la ley de desarrollo rural

emitir informes por landaberri según establece la ley de desarrollo rural

hori noski gure helburuetako bat da comentaba usted la ley diez barra mil novecientos noventa y ocho de ocho de abril de desarrollo rural

como un órgano de coordinación y colaboración interinstitucional además de

un decreto el decreto noventa y cinco barra mil novecientos noventa y ocho de dos de junio

las normas que decretaban cómo iba a trabajarse dentro de landaberri y dentro de esas funciones que usted también nos ha leído

algunos proyectos de ley de decreto y demás por otra parte también se dice en ese decreto de junio

a efectos de determinar la necesidad de que sean sometidos a su informe y en ese caso le tengo que señalar que el pleno de landaberri

dice textualmente el acuerdo informar favorablemente en la siguiente cláusula

todos aquellos programas planes y proyectos de ley y proyectos normativos del gobierno vasco relativos a la intervención y regulación de mercados agrarios y los relativos

y animal por todo ello se informan y se trabajan todos aquellos proyectos de ley y proyectos normativos que no quedan recogidos

y señalar evidentemente que informar no consiste en elaborar o redactar ningún informe de forma exclusiva y necesaria estrictamente sino que se trata de dictaminar su carácter favorable o no y es lo que hacemos en landaberri como usted sabe porque ha formado parte de ese órgano durante mucho tiempo eskerrik asko

señora consejera como usted sabe desde la sexto legislatura el grupo popular en el ejercicio de nuestra obligación y responsabilidad de control

y el cumplimiento de la normativa que se aprueba en esta cámara venimos solicitando los informes que va emitiendo landaberri

legislatura los informes emitidos por landaberri desde el uno de enero del dos mil trece al día de hoy

y nos ha contestado que no se dispone de informes emitidos por landaberri puesto que dicho órgano no elabora informes

sí que ha emitido informes emitió un informe a la ley de turismo ha emitido informes por lo tanto señora consejera mire yo le voy a dar porque esto ha sido un error en la respuesta voy a pensar que es un error humano

y porque hay informes que se han emitido y han venido con los proyectos de ley y algunos los hemos pedido y también se han traído por lo tanto esta respuesta no corresponde con la realidad y eso me lo tendrá que reconocer no sé cuál es el motivo pero lo voy a pasar por alto

es algo que la ley lo dice y lo dice con carácter previo y preceptivo esto no hay quien lo altere si no modificamos la ley

le decía nos da pie para insistir una vez más en que esta ley y algunos aspectos de esta ley requiere de una urgente reordenación

en la que se instaba al gobierno a que articule medidas para mejorar el funcionamiento de landaberri

con medidas y actuaciones para modificar landaberri se cambió la legislatura y nunca más se supo como usted

el grupo nacionalistas vascos y también nuestro grupo la modificación

esperamos que en esa ley de verdad se articulen instrumentos que realmente sirvan para coordinar las actuaciones que afectan al medio rural porque hoy por hoy creemos que es mejorable la actuación que landaberri hace

empiezo como finalizaba mi primera intervención señalando que

no significa en todos y cada uno de los casos que deba existir un informe sino que se pueda

eso no significa que en algunos casos no haya que elaborar un informe y estoy plenamente de acuerdo con usted por otra parte también no solo estamos de acuerdo en que es mejorable esta ley que ya está un poco antigua y quizá en algunos momentos realmente

ese informar favorablemente suponga redactar un informe o no y que tengamos que aclarar algunos conceptos que tenemos que modernizar esa ley

hemos planteado que a lo largo de esta legislatura vamos a proceder a la modificación de esta ley

y aclarar algunos de los aspectos que pueden quedar en la anterior ley sujetos a interpretación por tanto esa va a ser nuestra voluntad y por supuesto dado que es

iremos trabajando esa modificación para que nos lleve a tener una ley

donde órgano como landaberri tenga su actuación y nos planteemos si los órganos territoriales también tienen su actuación o no y en qué condiciones

adierazi nahi dut y lo segundo que quiero decir es que cuanto menos estoy perpleja

hace seis años el primer borrador de criterios que para quien no sepa es una suerte de guía de gestión de la rgi según palabras del propio ararteko

por primera vez y que sepamos en mayo de dos mil trece de esto hace cuatro años el ararteko emite una recomendación instando

y que permita a la ciudadanía defenderse el veintisiete de enero de dos mil quince de esto hace dos años

y once días fecha en la cual también lanbide manifiesta un compromiso de publicación de dicho documento txaro sarasua parlamentaria socialista realiza preguntas en diversos momentos de la pasada legislatura y concretamente

solicita la publicación de dicho documento yo misma cuando el compromiso de lanbide sigue sin cumplirse

pregunto qué pasa con este documento el día seis de febrero de dos mil diecisiete

se me responde que ese documento está en vías de ser publicado curiosamente hoy aparece publicado con nocturnidad y alevosía tengo aquí una copia de las propiedades del documento ha sido publicado ayer a las veintidós veintisiete con treinta y cinco segundos de la noche

porque mi trabajo sirve de algo o enfadada porque siento que aquí hay poco respeto no sé si se buscaba dejar a nuestro grupo parlamentario en ridículo o en silencio o se buscaba colgarse una medalla

que igualmente voy a seguir adelante porque ni yo considero que esté haciendo el ridículo aquí hablando ni yo considero que se merezcan ninguna medalla con este tema esta suerte de guía que son los documentos de criterio de lanbide viene aplicándose desde hace más

y además de incumplir con la legislación en materia de transparencia y buen gobierno contenía el que conocíamos por supuesto porque el nuevo ha cambiado

que son desconocidas por ellas mismas cosas curiosas como por ejemplo leo textual no se aceptará que una persona comparta una cuenta bancaria con otra persona que no esté incluida en su unidad de convivencia

que vivir en la misma vivienda por ejemplo otras cosas

aunque este este a nombre solo de uno de ellos porque no es una situación real

ya que nadie se compra una vivienda a medias con alguien con quien no le une ningún tipo de relación otras obligaciones importantes que han dejado sin sustento a miles de personas y familias como por ejemplo

la oficina no tiene que valorar si están justificados o no o si se aplica la prestación a la cobertura de necesidades básicas

se remitirá los gastos aislados que se detecten superiores a doscientos euros

supere la cantidad de doscientos euros en tres meses consecutivos es decir se establecen limitaciones sobre cómo la gente tiene que hacer uso

lo sepa pero además también se establece la prohibición de salir o de desplazarse fuera de la comunidad autónoma de euskadi sin permiso

en modalidad de inclusión social quince días personas que la cobran

no lo saben además de esto y por si acaso me dijeran que esto no ha sido de obligado cumplimiento en tanto en cuanto no ha estado publicado

o no se incumple la ley de transparencia en la página treinta y ocho de un documento publicado en esta misma institución se establece lo siguiente los nuevos criterios y los revisados se aplicarán a partir de la fecha de publicación de este documento es decir a todas las tramitaciones que se hagan a partir de la nómina de diciembre de dos mil catorce y ahora con nocturnidad y alevosía y hay que reconocerlo buena capacidad para manejar las instituciones a su antojo

esto esto en el que curiosamente todas estas cosas que yo estoy nombrando han desaparecido y como lo que le iba a preguntar con la publicación está respondido si se me permite me gustaría saber si lo publicado a día de hoy entiendo que provoca el decaimiento de lo que se viene aplicando hasta ese momento y si no lo fuera

pero además le quiero preguntar cómo va lanbide o cómo va usted como responsable política a compensar y a reparar a la ciudadanía

lo ha dicho la ciudadanía lo dice el ararteko lo sigue diciendo en el informe de dos mil dieciséis lo dicen los colectivos sociales lo dice este parlamento cuando al partido socialista parecía que esto le importaba

es muy triste la apariencia de que este gobierno según ustedes de la buena gestión solo reaccione ante una parte de la ciudadanía y ante la posible prensa pero más triste aún es que haya una parte de la ciudadanía entre la que está no se olviden las personas que protestan y que llevan más de quince días en huelga de hambre que parece que solo merezcan su desprecio eskerrik asko

de una forma diferente a la que voy a hacer porque

que me han realizado como consejera y a

acusándome de manejar las instituciones a mi antojo de actuar con nocturnidad y alevosía de hablar de medallas y de suponer que sus iniciativas

pueden ser ridículas o no bueno quisiera

comentarle que desde luego tengo un gran respeto por las iniciativas que cualquier grupo parlamentario realiza en esta cámara las comparta o no que mi obligación como consejera es atender a todas esas iniciativas e intentar buscar el interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas

cuando también me dice que merecen

me parece que es injusto y además que es falso porque cada uno puede ejercer sus derechos como mejor le correspondan o

sus intereses como crean conveniente yo solo lo que pido es respeto para todos los perceptores

que lo son muchos y que creo que flaco favor le hacemos con estas aseveraciones

a responder a la interpelación que realizó el once de enero a la que también vía escrito respondí ante una pregunta

como no podía ser de otra forma solicitándole un plazo para llevar a cabo una mejor respuesta de la misma

yo quería trasladarle que desde luego este gobierno en estos tres meses que lleva al frente

hemos realizado un análisis un diagnóstico de la situación y hemos visto priorizado y planificado cuáles son las iniciativas las que yo he detectado y los compromisos que el gobierno tenía

de anteriores legislaturas esta mañana

está trabajando en mejorar la gestión y la eficacia de las medidas que se desarrollan en el ámbito de actuación de lanbide este trabajo de reflexión es parte del compromiso de este gobierno en buscar la excelencia y la mejora de los servicios públicos que gestionamos

el pasado quince de diciembre este parlamento instaba al gobierno a promover un pacto que contemplara las modificaciones de la renta de garantía de ingresos

de todos los aspectos relativos a la renta de garantía que ya estamos llevando a cabo en el seno del departamento un informe que será presentado aquí el quince de mayo

sabemos que hay unos plazos que tenemos que llevar a cabo en la tramitación parlamentaria pero nosotros ya estamos avanzando y para ello estamos actualizando y mejorando y desarrollando diversas iniciativas dentro de las políticas sociales estamos cumpliendo con los acuerdos que se adoptan en este parlamento como no puede ser de otra forma

el pasado veintiséis de noviembre mi primer objetivo ha sido el de analizar como le decía y diseñar una serie de medidas para mejorar la gestión del departamento y para

que tengamos bueno que hayamos publicado ayer

señora guanche nosotros tenemos una planificación no me haga este gesto señor porque yo desde luego no les

hacia mí como persona y hacia esta institución a la que represento además y en relación con este tema ya le he respondido como le he dicho y durante este tiempo hemos ido avanzando a la hora

esta mejora en lo que es la tramitación y los criterios

le anunciaba que en estos meses finalizaría este trabajo

y lo hemos hecho yo si les molesta que seamos eficientes y que llevemos adelante nuestro trabajo en el plazo que nos hemos marcado

desde luego mi intención no ha sido ni como usted ha dicho ponerles en ridículo ni desde luego

dicho esto le informo que la definición y el conocimiento de los criterios de tramitación de la renta de garantía son un elemento clave

y servicio público en el departamento que estos criterios

ya que inciden directamente en la mejora de la gestión de dicha prestación y que además en este tiempo ya hemos realizado otra serie de medidas de mejora en lanbide y también de la mejora de la renta de garantía que ya hemos anunciado dentro de la planificación de los trabajos de este primer trimestre

y por eso hemos publicado en la página de lanbide estos criterios porque entendemos que eran nuestra obligación

yo tengo la responsabilidad de gestionar el departamento y lo que nosotros hemos entendido adecuado y conveniente

cuáles eran los criterios en la tramitación de la renta de garantía de ingresos estos criterios hacen referencia a las unidades de convivencia alojamiento

apátridas y personas con protección subsidiaria temas relacionados con los temas laborales trabajo autónomo trabajo por cuenta propia temas económicos patrimonio procedimiento valoración de derechos económicos y víctimas de violencia domestica

verá usted que estamos cumpliendo con nuestros compromisos de gobierno con el parlamento y con el ararteko y con la ciudadanía como así lo seguiremos haciendo

conocíamos su preocupación hemos sido respetuosos y sensibles a la hora de hacer y tomar las decisiones rápidas con el objetivo de que estos criterios de tramitación de la renta de garantía de ingresos fueran actualizados

de la legislatura pasada para publicarlos en el primer semestre del año dos mil dieciséis cuando lo hacemos rápido

porque tardamos señora guanche nosotros tenemos una planificación

y vamos cumpliendo en base al criterio al trabajo en equipo y a las necesidades detectadas

con el que el departamento se ha dotado eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea guanche andrea zurea da hitza

simplemente dejar constancia de cómo han sido las cosas aplaudo

lo que ya no aplaudo tanto y me llama bastante la atención es que curiosamente hay muchas cosas que vienen dejando a muchas personas personas con rostro con historias

muchos incumplimientos muchas suspensiones cautelares extinciones acumulación de infracciones que no saben que todo esto lo han tenido que cumplir y que se han pasado años sin poder cobrar que han tenido que ir a juicio hay cuestiones por ejemplo las salidas de la comunidad autónoma que

favorables a las personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos y a las que lanbide ha ignorado hay muchos procedimientos que a día de hoy siguen sin aplicarse entonces aplaudo que hayan publicado los criterios lo que quiero saber estos nuevos criterios donde ha desaparecido todo eso que generaba un conflicto en la ciudadanía que viene denunciando las malas prácticas de lanbide en los últimos años quiero saber

no porque yo tenga una intención especial de discutir con usted aquí

de ingresos y creo que eso pasa por ahí y siento si le ha molestado la expresión de la nocturnidad y la alevosía pero creo que hay un documento publicado a las diez de la noche

no obstante si a usted le molesta yo no tengo ningún problema en considerar la posibilidad de que yo me esté equivocando y esto no lo haya hecho usted para fastidiarme a mí no me considero tan importante de verdad tampoco me considero tan torpe ni considero

no haya tenido absolutamente nada que ver con la publicación de anoche pero en cualquier caso eso queda ya en otro ámbito porque lo importante es que esto está publicado sí que me sorprende

no he podido mirar mucho me sorprenden dos cosas la primera es que respecto a la respuesta que usted me daba en relación a la publicación de este documento usted me decía que se prevé que la revisión finalice en los próximos meses esta respuesta está emitida el veintiuno de marzo

yo insisto me sorprende además de esto una cosa que he detectado en la página veintiuno de este nuevo documento

plantea algunas cuestiones en las que no me quiero meter de fondo porque quiero estudiarlo con tranquilidad pero que me preocupa porque a mi juicio dejan fuera de la posibilidad de acceder a la rgi a las personas que se encuentran en situación irregular es la obligación

tas tres meses de residencia en el estado pregunto es otra de las

a mí personalmente la ley de garantía de ingresos me parece algo a defender el sistema de garantía de ingresos me parece algo a cuidar pero lo que no me parece

que eso no lo estamos haciendo creo que sus tragaderas son amplias yo no trago

algunas formaciones políticas realizan en base a lo que es la mejora de la renta de garantía de ingresos sinceramente creo que a mí sí que me parecen insultos que me diga que manejo las instituciones a mi antojo

y además muy grave que desde luego no comparto y creo que además es injusto yo llevo como le decía antes

noviembre siendo consejera de este gobierno y no me puede pedir milagros

sí que he puesto medidas importantes que creo que van a mejorar el acceso de la ciudadanía

la mejora de la renta de garantía su formación etcétera que seamos eficientes y que lo hagamos rápido les molesta pues lo siento mucho nosotros vamos a seguir trabajando con este mismo rigor y con esta misma intensidad para seguir avanzado que es

colocado en esta responsabilidad que los criterios que se van a aplicar son los que están publicados por supuesto es que eso es obvio no hace falta ni preguntarlo y que

apoyo que el partido popular va a dar a los presupuestos tengamos que estar en cada una de las intervenciones

justificándo no me parece que está fuera de lugar los presupuestos llevan su tramitación

y desde luego para nada señora guanche para nada en este caso se ha trabajado con el partido popular en cuanto a lo que tiene que ser los criterios de tramitación de la renta de garantía de ingresos hombre y también me sorprende y me molesta

defienden el sistema de protección social que parece que es lo que me está siempre reprochando cada vez que sale a la tribuna porque le quiero recordar que

o más este país ha contado con un sistema de protección social que ha ido mejorando paulatinamente con la incorporación y la apuesta decidida

que eso es algo que hay que poner en valor y que por un lado y por el otro que estemos todo el día poniendo como

en los sistemas sociales me parece que de verdad flaco favor vamos a hacer para seguir avanzando creo que contamos

envidiable en el estado ninguna comunidad autónoma ninguna tiene un modelo de protección social como el que tiene euskadi reconocido por todas las comunidades autónomas

a nivel europeo contamos con unos servicios sociales que también lo son y que también son reconocidos incluso a la propia lanbide a pesar de la ineficacia que algunos

de la falta de trabajo y de rigor que también otros pretenden acusarla creo que es un modelo de ejemplo de servicio de empleo

que todos deberíamos apoyar en positivo para avanzar simplemente yo quisiera trasladarles también que este gobierno ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones y hoy también

por el sistema de protección de garantía de ingresos porque creemos que es una medida que afecta a los ciudadanos que en peores situaciones se encuentran que está mejorando la calidad de vida de esas personas que les está ayudando para que puedan tener una oportunidad

tenemos que seguir apostando por esa renta de garantía de ingresos que es lo que hacemos tenemos el compromiso de llevar a cabo una reforma esa reforma tiene que ser

hoy y en el futuro y espero señora guanche que las aportaciones que su grupo en el trámite de mejora de la propuesta que el gobierno traiga a este parlamento mejoren

de una forma importante si puede ser la propuesta que el gobierno presente

espero su trabajo para que

el modelo sea cada vez mejor y satisfaga las necesidades que

señora uriarte en el último mes hemos tenido conocimiento de que en las escuelas públicas se ha realizado una prueba diagnóstica con documentación

y heteropatriarcal cuáles son las medidas que el gobierno vasco adoptará para asegurar la retirada de esa documentación
el diseño e implantación de una documentación que no sea discriminatoria hacia niños niñas y sus familias en el ámbito de la educación eskerrik asko eskerrik asko arana andrea

y que se integren los aprendizajes de todas las competencias entiendo que su pregunta debe estar referida a las pruebas de evaluación de diagnóstico que se han realizado en todos los centros públicos y privados de la comunidad autónoma del país vasco y en las que ha participado el alumnado de cuarto de educación primaria y segundo de la eso

de fechas quince y diecisiete de marzo que ya han sido convenientemente analizadas y contestadas

abiertos a propuestas de mejora que se nos remiten y que nos permiten mejorar los cuestionarios de futuras evaluaciones eskerrik asko uriarte andrea arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko voy a empezar leyendo algunos fragmentos del documento que mencionaba en la pregunta para que todas sepamos de qué estamos hablando cito textualmente en las primeras preguntas te pedimos información sobre tu padre y tu madre en el caso de que tu familia esté formada por dos padres o dos madres deberás responderlas teniendo en cuenta tu situación familiar

personas adultas a su cargo están totalmente excluidas el texto sigue por ejemplo si tienes dos padres la información sobre el primero deberás hacerla las preguntas donde pone padre evidente

que tengamos circulando este documento por las escuelas es realmente grave señora uriarte muy grave el mensaje es claro lo normal es tener padre y madre si no es así tu niño o niña

simbólicamente para los niños y las niñas es una interpelación es un cuestionamiento y un aviso sobre lo que significa todavía hoy salir del modelo familiar

tienes que adaptarte tienes que simular que tienes una familia normal gravísimo esta iniciativa

las prácticas institucionales que todavía hoy vulneran los derechos de las personas trans

y de la sociedad en su conjunto y por supuesto de los niños y niñas como ciudadanas en pleno derecho y con un estatus jurídico específico para su atención y protección que en este caso

sino que se les solicita que complementen el mismo adaptando su realidad familiar al modelo tradicional y heteropatriarcal que subyace en el documento en el capítulo primero de la ley de atención y protección a la infancia y adolescencia se establecen

y el derecho a la igualdad esto no se cumple el ámbito de la educación es clave para el impulso y promoción de nuevos principios y valores en la sociedad

por motivos de orientación sexual identidad de género o de los diversos arreglos familiares mire usted como ya sabe el servicio berdindu denominado bendindu eskolak brinda asesoramiento y formación al profesorado en centros educativos con interés

también ofrece apoyo técnico y formación básica personalizada al profesorado en centros con interés

o curricular con el ánimo de mejorar las políticas que deben asegurar los derechos de la población lgtbi como establece la ley

debemos señalar que tanto la prestación inicial de servicio como en esta segunda línea de trabajo

con interés entendemos que el ejercicio y cumplimiento de los derechos no tienen que depender de la voluntad de los profesionales de un centro educativo

individuales el acceso a los mismos genera condiciones de desigualdad entre los centros educativos y los niños lo sufren consideramos que los derechos deben garantizarse a través de una política institucionada

en las aulas de creencias o principios individuales que sean contrarios a los mismos es responsabilidad del gobierno vasco y del departamento de educación la retirada inmediata

a rellenar un documento en el que se le vean reconocidas sus familias esto significa negar cuestionar de forma tácita

con el objeto de que se clarifiquen todos los aspectos que les puedan generar dudas y preocupaciones les comento

educación primaria se dan explicaciones con el ánimo de facilitar la contestación del alumnado cuyas familias están formadas por dos padres o dos madres habían tenido dificultades en los años anteriores el anexo introductorio no menciona ningún momento a las familias separadas el programa informático ha sido realizado

el criterio trasladado a las personas evaluadoras permite que en nuestra aplicación informática las informaciones de los progenitores queden sin ser contestadas

en que sea obligatoria su respuesta en todo caso si en algún caso se hubiera dado tal indicación no se habría ajustado al procedimiento establecido isei ivei garantiza que el programa informático ha posibilitado y seguirá posibilitando que sea contestado por todo tipo de familias en definitiva

lo que no impide que siempre estemos dispuestos a introducir mejoras en los cuestionarios
para lo que podríamos tener en cuenta las sugerencias que nos salgan siempre que se refieran a aspectos concretos de las pruebas o cuestionarios eskerrik asko uriarte andrea

a hacerle una pregunta señora consejera sobre el plan estratégico de convivencia escolar porque nosotros sabemos que en el país vasco en euskadi

que los esfuerzos están muy diversificados tenemos por ejemplo el plan que sostienen las ikastolas pero que se aplica sobre ellos

todos los esfuerzos muy compartamentalizados conocemos el plan de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección y maltrato acoso y abusos sexuales conocemos el convenio firmado entre educación y el departamento de seguridad la guía contra el maltrato

muchos instrumentos pero no los vemos todos reunidos en uno solo que un liderazgo por parte de la administración en estos momentos tenemos este otro instrumento que es el plan estratégico de convivencia escolar y querríamos saber
su postura al respecto muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

señora bengoechea nuestro sistema educativo tiene la finalidad fundamental de aportar a cada uno y cada una de sus ciudadanos y ciudadanas herramientas personales sociales culturales

con valores y principios éticos que contribuyen a la dignificación de nuestra condición humana y alabanza hacia una sociedad en que todos cabemos y de la que todos nos sentimos parte

zuk aipatu duzu la trayectoria de nuestra comunidad en el ámbito del desarrollo de la convivencia positiva en nuestros centros escolares

en el año dos mil primer programa de convivencia educativa en los centros de la comunidad autónoma en los años dos mil siete y dos mil diez programa para la convivencia la paz y los derechos humanos la guía de actuación en los centros educativos ante el acoso escolar por primera vez en el curso dos mil cuatro dos mil quince

decreto dos mil uno dos mil ocho de dos de diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco en el año dos mil catorce el plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo

finalmente este curso escolar se ha conformado un grupo de trabajo en el ámbito de la convivencia que está elaborando lo que será el plan de prevención y detección ante el acoso escolar teniendo en cuenta todo el recorrido realizado es decir con esto le indico que en el desarrollo de nuestras competencias son diversas iniciativas las que desde hace largo se vienen desarrollando en euskadi y que tendrán

nadie duda de que ese sea la vocación del departamento de educación es que no podría ser de otra forma es la vocación de cualquier sociedad civilizada sin embargo como le digo usted también me ha mencionado las distintas acciones y actuaciones que se están llevando a cabo pero nosotros echamos de menos

del departamento para tener una única forma de actuación

se nos ha ofrecido el plan estratégico de convivencia escolar

en este ámbito oigo mucho hablar de madrid madrid madrid vamos a ver quién compone este plan estratégico se lo leo como está en el documento

canarias cantabria castilla la mancha castilla león extremadura galicia la rioja

ceuta y melilla entonces a mí lo que me da pena es que no estemos nosotros aquí si quiere primos interpares los mejores entre los iguales pero me parece que no participar en este tipo de cosas es una pérdida vamos a ver aquí somos dos millónes ciento cincuenta mil personas trabajando juntas y

en la que por lo menos por lo que le he leído son treinta y nueve millónes de personas pensando juntas discurriendo juntas e intentando llegar al resultado más óptimo y nosotros

nos mantenemos aparte encerrados sobre nosotros mismos pensando que somos el no va más del no va más y siendo incapaces de hacer eso que por otra parte yo le he oído muchas veces al lehendakari elogiar

señora consejera nuestra postura es que tenemos una personalidad lo suficientemente fuerte para no sentirnos amenazados por un diálogo y una inclusión

son de todas estas personas de esos treinta y nueve millónes de habitantes por favor incluya también los esfuerzos de su departamento muchas gracias

nuestro último paso es el de elaboración del plan de prevención y detección ante el acoso escolar

en conexión con el plan de convivencia de centro y cuya finalidad primordial será de dotar al alumnado de las herramientas necesarias para aprender a convivir en este sentido y como han trasladado el compromiso de mi departamento es firme y decidido en la búsqueda de soluciones y ante la cuestión que usted plantea de una forma usted se ha dado la contestación que es la que dio el propio ministro

que son las que tienen las competencias y en el desarrollo de las mismas desarrolla sus propios planes

así lo indicaron en otro caso nos encontraríamos ante una invasión de competencias además de no conllevar a un apartado de recursos por nuestra parte nosotros ofrecemos lo nuestro pero una cosa es trabajar pero nuestro primer compromiso

a mí para hablar en el día mundial de la salud de algunos problemas de salud vamos a la tarea

el proceso de gestión de la prometida construcción del centro de especialidades de zalla es un ejemplo de ineficacia y de cómo uno se embarulla para hacer de los problemas pequeños un problema grande

un problema grande que tiene desconcertados al equipo de profesionales médicas y enfermeras del actual centro de salud de zalla al ayuntamiento de zalla y ayuntamientos de la comarca enkarterri

de sus compromisos esta legislatura efectivamente en el dos mil siete se prometieron desde la consejería de salud gestionada por el partido nacionalista vasco tres centros de alta resolución para bizkaia gernika

y zalla los dos primeros el segundo como hospital

no sin pocos problemas pero en relación con el nuevo centro de especialidades de zalla no se ha hecho absolutamente nada hasta la fecha de hoy bueno perdón se ha invertido en el dos mil diez

se han perdido qué piensa hacer señor consejero

que se ha reservado en los presupuestos este año para el centro de salud de zalla eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

su preocupación actual por el centro de salud

me lo preguntó usted en la comparecencia de presupuestos donde yo expuse que se iba a hacer

nuevamente hoy preocupación muy reciente porque el programa electoral de elkarrekin podemos no recoge ninguna infraestructura

no por preguntar se van a poder ejecutar antes como seguro que usted conoce visité personalmente el centro de salud de zalla y no percibí

problema entre el personal el año pasado estuve en la campaña electoral en zalla

a mi partido se ha recibido en el departamento de salud

no por el consejero por la delegada territorial de bizkaia que es a quien corresponde

solicitando un hospital veinticinco firmas en una recogida de firmas o sea un montón de hojas vacías y hoja y media con veinticinco firmas el gobierno vasco tiene previsto de un nuevo centro de salud y especialidades en zalla

esta posibilidad y se decidió que el proyecto se abordaría cuando las circunstancias de la ubicación y la coyuntura económica lo aconsejaran

los terrenos cedidos por el ayuntamiento de zalla están calificados por la agencia vasca ura desde dos mil trece

como inundables y continúan así lo que ha hecho inviable su construcción hasta la fecha

cuando se puedan abordar actuaciones para la construcción del nuevo centro mientras tanto en el presente ejercicio

en el proyecto presupuestario que como sabe usted ha consignado este departamento

gracias por la vehemencia de la contestación hay que estar acostumbrado también a que se le pregunten cosas de vez en cuando

no hay gente de podemos en el centro de salud de zalla ni en el ayuntamiento ni en la plataforma ciudadana no se preocupe por eso

el sitio cómo funcionan y hemos estado en el centro la semana pasada

y hemos estado también con los técnicos de ura la gestión es inadecuada poco democrática y el futuro todavía no lo sabemos bien es cierto que se han aprobado sorprendentemente doscientos mil euros más que ha presentado el pp como enmienda de esa inversión

y que tiene que ver con construir el centro prometido conocemos los problemas que informó en su día la agencia vasca del agua ura

problemas hoy solucionados por escrito oficial conocemos que han cambiado las condiciones de accesibilidad de zalla que probablemente haya que remodelar el tipo de centro de especialidades que el departamento de salud va a cometer

es un mal ejemplo de las capacidades de gestión de nuestro departamento de salud es un mal ejemplo señor consejero creemos que hay que estar más con la gente explicar los planes en marcha informar y aunque se cambie de alcalde

mantener las promesas realizadas y en este caso son más que promesas son necesidades reales para garantizar una asistencia sanitaria digna a una de las zonas de euskadi junto con la margen izquierda con más alta tasa de mortalidad y movilidad de todas las causas según los mapas consultados en la propia web del departamento de salud a usted le gusta decir en su discurso

uria jauna celebro que haya ido usted a zalla la semana pasada yo he ido varias veces en la legislatura pasada he ido varias veces no sabe usted la representación del conjunto de vecinos de enkarterri

no la tiene mire usted las selecciones no la tiene nos conocemos desde hace tiempo es la primera vez que me pregunta usted por zalla salvo lo que preguntó en presupuestos cuando anunciamos nosotros que reservamos una partida presupuestaria

una enmienda de dos millónes de euros porque como no sea para construir un puente sobre el cadagua

dos millónes de euros en ocho meses hay que tener un poquito de responsabilidad presupuestaria mire el centro de salud y especialidades de zalla se va a abordar para las necesidades de los vecinos de zalla y de enkarterri se va a abordar en tiempo y forma y se va a abordar cuando el terreno

supongo que se lo han dicho a ustedes los técnicos de ura no está todavía ejecutada y se prevén

zurea da hitza gracias presidenta consejera consejeros buenos días de nuevo

no es la primera vez en las últimas pasadas legislaturas este parlamento conoció diversas iniciativas y comparecencias en torno

se desplegaron por parte del gobierno vasco de negociaciones para primero tras la

su visión estratégica y su andadura inmediata lamentablemente en el ámbito y en el periodo de la capitalidad cultural san sebastián dos mil dieciséis se dio una mala noticia se dio una mala noticia hubo muchas buenas noticias

de la ruptura de las negociaciones con ese jarro de agua fría del señor olano

pero estamos en otra legislatura por parte de su mandato desde luego ya hablamos de eso de una manera general en su comparecencia puntual no quiero decir puntual

para que usted analice la situación y sí que me gustaría saber qué actuaciones tiene previsto emprender el gobierno vasco en relación

egun on guztioi señor barrio efectivamente han sido varias las ocasiones en las que nos ha planteado esta misma pregunta y además siempre en términos muy similares la comparecencia ante la comisión de cultura política lingüística y deportes

qué teníamos previsto con respecto a chillida leku y en la comparecencia sobre presupuestos el dos de marzo puso el acento en que no había encontrado en el anteproyecto

y hoy voy a insistir en mi respuesta y no voy a hacer sino reiterar lo que ya le he dicho en las dos ocasiones anteriores

un esfuerzo intenso y prolongado de relación y negociación con las instituciones guipuzcoanas y con la representación de la familia del artista

que asegurara la apertura de chillida leku y permitiera la gestión de su patrimonio artístico el gobierno lideró aquel proceso por entender

consistencia y riqueza a la oferta cultural de euskadi y porque creyó ver en los responsables institucionales guipuzcoanos un interés por su desarrollo

pero a pesar de los importantes avances que se lograron no fue posible llegar al acuerdo entre el gobierno la diputación foral de gipuzkoa y la familia chillida en ese desenlace fallido fue determinante la oposición de la diputación foral de gipuzkoa

que suponía la operación decidió quedar al margen de la negociación

que esa decisión era la más adecuada para defender el interés general del territorio guipuzcoano el gobierno acato desde el respeto institucional

debe contar necesariamente con el compromiso de las instituciones territoriales correspondientes en el caso de chillida leku la diputación foral de gipuzkoa por lo tanto
vasco en estas condiciones no tiene previsto retomar este proyecto de forma unilateral gracias eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

no es una buena noticia no no es una buena noticia porque

tiene que en algún momento que suponer chillida leku para nuestro

asentamiento cultural ya lo es pero lo tiene que ser mucho más no es una buena noticia que no tenga esa pretensión ha hablado de unilateral dentro de un momento le formularé alguna pregunta más concreta pero es que chillida leku vamos a ver y

un informe muy completo y que además fundamentó la negociación la pasada

correr riesgos con este ámbito no es un museo ya lo dice chillida leku es un espacio viable visitable pero no es un museo es otra cosa

sin precedentes en el mundo de la mano de uno de los artistas más importantes los escultores más importantes de la historia algo tiene que haber

y tiene que serlo y tendría que serlo permanente y dinámico esa es la clave

monográfico pero no un lugar aislado para los creadores como se dice ese es el concepto que tendríamos que tener en relación con la ambición el futuro

viable a largo plazo además que ese es el elemento fundamental pero a largo plazo pero también tiene riesgos a corto plazo

en euskadi y no hay nada igual en españa ni en europa hay otras cosas importantes

algo tiene que haber y yo sí que me gustaría preguntarle

han hablado con la diputación foral de gipuzkoa para que cambien su posición en relación con este tema porque tengo que decirle que

y fue en periodo electoral cuando el señor olano se echo atrás ahora no estamos en periodo electoral se pueden madurar algunas de las cuestiones
ha hablado usted piensa hablar con el señor olano y convencerle gracias eskerrik asko barrio jauna

barrio jauna el gobierno tiene claro que una de sus funciones los que consideramos proyectos y eventos tractores tractores por la importancia que tienen para el desarrollo de la actividad cultural y también por efectos de todo tipo especialmente culturales que tienen en su entorno nuestro compromiso

y ha sido una constante en las políticas culturales que se han desarrollado en euskadi esa es la razón por la que el gobierno decidió en su día apoyar y participar

la quincena musical donostiarra el museo guggenheim el apoyo al museo san telmo

el proyecto del valle salado de añana la capitalidad cultural europea de donostia en dos mil dieciséis o más recientemente el centro internacional de cultura contemporánea tabakalera

de la mano de las instituciones forales en algunos casos de los ayuntamientos correspondientes de la administración central del estado o incluso de la iniciativa privada

en el que está incluido chillida leku tiene carácter tractor y así lo hemos reiterado en todos los foros en los que estamos presentes por lo tanto

podríamos volver a reconsiderarlo pero solo desde las premisas que he comentado previamente

a todos señora consejera en el primer pleno de esta

en esta cámara sobre este mismo asunto sobre lo que es un servicio esencial

de lo dispuesto en el artículo diecisiete de nuestro estatuto de autonomía es un servicio de nuestra competencia un servicio que es muchísimo más que un número de teléfono porque su función es coordinar a todas las instituciones

y un servicio que claramente tiene carácter público como se ha dicho en esta cámara la última vez por usted misma a propósito de la presentación de los presupuestos de su departamento en el que en esa comisión literalmente señalaba

lo gestionaba la propia dirección de emergencias es decir que su gestión era pública y nosotros compartimos ese carácter

porque como hemos dicho en muchas ocasiones un servicio no deja de ser público porque no se preste directamente por funcionarios o por personal de la administración

sino que sigue siendo público aunque ese servicio esté subcontratado como está este y su gestión o la prestación se hace a través de la empresa

que es la adjudicataria del último concurso estamos como decía ante un servicio

un servicio de atención al público en momentos complicados en momentos de urgencia y de emergencia y que por lo tanto si todos los servicios públicos tienen que ser eficaces en este caso la calidad es tiene que ser una de sus características y lo es

es una de las características de este servicio y lo es fundamentalmente por sus trabajadoras por la plantilla y hablo en femenino porque fundamentalmente son mujeres las que trabajan en este servicio mujeres que son capaces de empatizar con quien está llamando en ese momento de dar una respuesta humana eficaz y rápida en momentos

una plantilla con una gran profesionalidad como usted mismo también reconoció señora consejera en esa comisión de hacienda

que le quiero trasladar es dado la importancia que las trabajadoras tienen en la prestación de este servicio dado que son una pieza fundamental en el mismo si se ha reunido con las mismas

conoce creemos que no se ha reunido pero queríamos que nos lo confirmara porque desde que se aprobó en el parlamento la proposición no de ley

trabajadoras y como le decía tampoco ni usted ni su departamento se han puesto en contacto para celebrar alguna reunión o para intentar solucionar los problemas que planteamos

de seguridad para fijar una reunión pero la contestación recibida ha sido

la agenda estaba muy completa y yo le quiero cuestionar señora consejera ni usted ni el viceconsejero de seguridad

para poder reunirse con las trabajadoras de verdad que no pueden reunirse con las personas que atienden a este servicio

ya le digo a nosotros nos han trasladado que no ha sido así sí quiero confirmar si es verdad que no se han reunido y en el caso de que no lo hayan hecho la razón de verdad su agenda está tan repleta como para no sacar media hora para estar con unas personas que son pieza fundamental en ese servicio

por las que se trajera aquí a esta cámara el debate sobre el servicio ciento doce era precisamente dar a conocer la situación del servicio

porque no habían sido recibidas y parece que a día de hoy seguimos en la misma situación también se pusieron una serie

en ese pleno y se aprobó finalmente una enmienda de transacción entre el grupo elkarrekin podemos y nuestro grupo en el que se instaba a su departamento hacer una serie de cuestiones y se plantearon también

la situación de la plantilla una situación que es importante

la plantilla ya se lo dijimos es insuficiente en este momento para la atención del servicio por ello hay ocasiones en las que hay llamadas que no son atendidas

suficientes y en este caso el tiempo de respuesta es vital vital porque en muchos casos urgente que se mande el servicio que se trate en cada momento y vital por la situación de angustia por la que está pasando la persona que llama en ese momento y que cualquier minuto de retraso le parece un siglo el número de llamadas como digo ha ido aumentado y sin embargo la plantilla lejos de mantenerse estable incluso ha disminuido

la necesidad que se cree una bolsa de trabajo para bajar y sustituciones porque en este momento cuando son las propias trabajadoras entre ellos y perdiendo periodos de descanso como tienen que cubrirse y por ello también le queremos cuestionar señora consejera sabe usted que hay turnos en el servicio de atención

ehun eta hamabi en los que no se cubren todos los puestos porque la actual adjudicataria carece de un servicio de retén

se va a obligar a que este servicio de retén se ponga también solicitábamos que en el próximo pliego se contemplase la subrogación de los trabajadores

de esta manera se produciría una estabilidad en el empleo y un mantenimiento en la calidad del servicio porque

y la preparación del personal es muy importante además de la preparación la tenencia de otras cualidades es tan importante que en el propio pliego exige que esas trabajadoras tengan una serie de conocimientos en la anterior contratación sucedió que no se produjo la subrogación y es verdad que se continuó con la misma plantilla porque evidentemente son las que tienen la capacitación

pero como no estaba la subrogación mantuvieron su empleo pero en peores condiciones lo cual supone una situación

por eso creemos conveniente que para que el servicio continúe siendo un servicio de calidad que la nueva contratación como le digo siga la misma plantilla pero sin perder derechos

lo permite y por ello queremos también plantearle señora consejera si se contempla la posibilidad de la subrogación en esos nuevos pliegos porque en esa comisión

a la tramitación de los pliegos y queremos preguntarle en qué fase está esa tramitación y esa redacción entendemos que todavía no ha salido a concurso ese servicio porque no se han terminado los pliegos pero queremos preguntarle para cuándo está previsto pliegos sean redactados y el servicio salga a concurso en este momento por lo tanto el servicio está en prórroga o así lo entendemos nosotros y queríamos también cuestionarle

y operativas se ha prorrogado el servicio si existe un documento en el que se recoja dicha prórroga así como las condiciones cuantitativas y cualitativas del mismo como le decía señora consejera tras la aprobación en el parlamento de esa enmienda de transacción

una serie de actuaciones y por ello queremos
que aquí nos explique que ha hecho el gobierno vasco para dar cumplimiento a ese mandato del parlamento muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea bien atendiéndome a la pregunta que usted me planteaba

señora llanos las reuniones con los y las trabajadoras del servicio de atención telefónica del

son habituales son habituales entre el personal

reuniones a nivel operativo para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la prestación del servicio lógicamente para ello están establecidos los canales

por tratarse como usted bien ha dicho de un servicio público esencial sujeto a unos parámetros de gestión y evaluación profesionales bien estructurados en el servicio vasco de atención a emergencias repito como usted ha dicho es un servicio de atención telefónica a las llamadas de emergencia que se reciben en el es un servicio público adscrito a la dirección de emergencias dentro del sistema vasco

laboral gestionado a través de una empresa subcontratada en estos momentos se están tramitando los pliegos de condiciones para volver a licitar el servicio

cuándo y cómo mejor corresponda a aquella empresa que mejor cumpla con los requisitos establecidos y este es el motivo por el que en respuesta a su pregunta concretamente si me voy a reunir o si el departamento se va a reunir con las trabajadoras le tengo que ser sincera y le voy a decir que no nos vamos a reunir con las trabajadoras

ni siquiera tampoco con la empresa no nos vamos a reunir para tratar cuestiones que sean ajenas o que puedan interferir en el proceso de contratación y no lo vamos a hacer

lanzar la contratación siguiendo lo que establece la propia

de administraciones públicas por tanto lo que nos compete como bien decía usted es definir

establecer las bases con la suficiente seguridad jurídica

y efectivamente adjudicar aquella empresa que mejor cumpla con esas condiciones establecidas entendería usted señora llanos que condicionáramos ese proceso

a la propia contratación con acuerdos o cláusulas pactadas previamente con trabajadores o incluso con una determinada empresa

ni lo permite la ley la ley es clara en este sentido y dice que las cláusulas del pliego de condiciones no pueden en ningún caso suplantar obligaciones

que las condiciones laborales por tanto se deben regular dentro del ámbito de la negociación colectiva y no a través del pliego de condiciones de una contratación y se deben regular dentro del ámbito sectorial correspondiente y en el ámbito de unas relaciones normalizadas entre la empresa adjudicataria

siento decirle pero este es nuestro punto de vista y respecto a la proposición no de ley aprobada el pasado veintiséis de enero tengo que decirle que buena parte de esos puntos también son un brindis al sol y lo son porque desde el punto de vista jurídico no son aplicables al servicio afectado proponen que se incluya el servicio dentro de la estructura organizativa pública desde el punto de vista jurídico y usted lo ha expresado aquí

es imposible publificar lo que ya es público lo que no está privatizado

a la estructura organizativa pública pertenece al centro de coordinación de emergencias de euskadi adscrito a la dirección de atención de emergencias y meteorología por tanto ya está administración general y de la estructura pública lo que nos corresponde como le decía es adjudicar la prestación del servicio a la empresa que mejor garantice el servicio hacían referencia en la proposición no de ley aprobada también

al artículo veintiséis de la reforma de la ley de gestión de emergencias

se referían al citado artículo para argumentar y reclamar que se incluya al personal que atiende

organizativa pública de atención a emergencias pero en realidad lo que dicho artículo propone es que se

pública que permita una mayor eficacia en la prestación del servicio del sistema de atención a emergencias el artículo en cuestión no predetermina

por el tipo de organización que pudiera ser aconsejable y desde luego

que dé a entender que la fórmula actual de subcontratación no se ajusta o no cumple con las exigencias del servicio otras de las cláusulas que ustedes proponen choca frontalmente también con la

de contratos de administraciones públicas la administración no puede exigir como condición contractual que la empresa adjudicataria se vea obligada a aceptar condiciones laborales previamente pactadas usted lo sabe tampoco exigir que una empresa aumente o disminuya la plantilla lo que sí hace la administración es establecer cuál es la estructura de personal suficiente necesaria para atender el servicio que se está requiriendo

en el pliego de condiciones en las cláusulas de contratación tanto para lo que supone la prestación ordinaria de este servicio como para aquellas ocasiones en las que es necesario los refuerzos o en aquellas ocasiones que son necesarios esos refuerzos porque son situaciones ya planificadas o bien porque sean situaciones excepcionales

de condiciones plantean también ustedes una certificación profesional que acredite la particularidad del trabajo que se realiza y desde luego

no está en cuestión la capacitación profesional de las trabajadoras al contrario la valoración que hace el departamento sobre la manera de ofrecer el servicio es profesional y positiva

la formación exigida a las personas que atienden el servicio es un requisito que se recoge también ya en los pliegos de condiciones pero es que además

exigen existen las auditorías tanto internas como externas una exigencia que por otra parte está plasmada insisto en los pliegos de condiciones

modificar el pliego de condiciones en el sentido

proponen ustedes que se incluyan en el actual catálogo nacional de cualificaciones profesionales

señora llanos habría que plantear la modificación precisamente plantea la modificación

cualificaciones y planteárselo lógicamente en el gobierno de españa y además hay que plantearlo con las suficientes

cautelas o estudiando bien los términos de la propuesta no vaya a ser incluso pueda ocurrir que el personal que hoy está atendiendo estos servicios pudiera verse

la propuesta usted lo ha dicho e insisto el servicio de atención a las llamadas de

emergencias se encargan de derivarlas a los servicios de atención correspondientes más del veinte por ciento son atendidas por personal médico de osakidetza y no menos de otro quince por ciento por servicios de de interbiak los servicios de mantenimiento y atención de las carreteras de diputación bomberos

buena parte una parte importante también por la ertzaintza por supuesto por policías

accidentabilidad el ciento doce es el teléfono nuclear de

y así lo va a seguir siendo la responsabilidad insisto del departamento en estos momentos y del gobierno es elaborar esos pliegos de condiciones con

con seguridad jurídica dar pasos seguros dar pasos realistas seguir garantizando las mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa que resulte adjudicataria garantizar que esas condiciones sean buenas

acorde y que sea un buen servicio para la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea llanos andrea zurea da hitza

gracias de nuevo señora presidenta señora consejera de su respuesta le agradezco una cosa la sinceridad usted deja patente con esa sinceridad además

yo creo que una de las características no sé si en su vida personal pero desde luego que en su vida política en la anterior legislatura ha quedado palmaria

usted ya se ve que reunirse y dialogar pues no es algo que le guste mucho no ha dialogado con las centrales

sigue teniendo todavía a día de hoy manifestaciones todas las semanas y ya ha dicho clara y meridianamente no se va a reunir con las trabajadoras mire yo creo que los políticos

y un gobierno que se vanagloria precisamente de la importancia de las personas que diga de manera taxativa que

son ciudadanas vascas que quieren plantear un problema piden una reunión para plantear ese problema y se diga taxativamente a mí me da igual yo no las voy a recibir

por lo menos del carácter de su departamento porque mire yo he tenido responsabilidades de gobierno y cuando iba a salir un servicio que era el servicio de ayuda a domicilio

y era un servicio también que se prestaba de manera indirecta escuché cuáles eran sus peticiones junto con los técnicos que luego iban a dar ese servicio y no influyó en nada

adjudicataria del servicio pero ayudó mucho precisamente a quien redactó el pliego de condiciones el saber qué era lo que funcionaba y no funcionaba en ese servicio

positiva y no de manera ilegal precisamente porque además nosotros ahí en esa iniciativa planteábamos

claro que es un servicio público pero el servicio se puede prestar de manera directa por funcionarios

de qué salía qué era más eficiente para la administración desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo que fuera un servicio público o que fuera un servicio público prestado directamente por funcionarios o que fuera un servicio público prestado a través de una empresa

yo no hago ningún prejuicio este grupo no hace ningún prejuicio evidentemente si cuantitativa y cualitativamente es mejor que esté prestado como se está prestando en este momento nosotros estamos totalmente a favor eso sí que sea un servicio que no pierda ni un ápice de calidad porque esté prestado a través de una empresa y no directamente por funcionarios públicos y para que no pierda ni una merma de su calidad es necesario que las condiciones de trabajo

cuáles sean las condiciones en las que trabajan esas personas influye de manera directa de manera directa en el servicio

una cuestión sí que le quiero preguntar usted ha dicho que no se van a reunir lo que no sé es porque su viceconsejero

directamente que no hubiera dicho problemas de agenda y sí le quiero hacer una pregunta no se han reunido con la empresa con la empresa no se han reunido porque este grupo tiene noticia de que sí pero si usted me dice que no pues será

le reitero la cuestión y luego habla de la redacción del pliego de condiciones oiga que no son las tablas de moisés que existen

que además cueste tanto redactarlo sobre todo teniendo en cuenta que no van a introducir ninguna novedad

ninguna de las demandas hechas por las trabajadoras porque ya ha dejado usted claro y meridianamente que usted

que son las primeras prestatarias del servicio y que por lo tanto debieran ser

funcionará de manera óptima eso a usted le da exactamente igual pues bueno nosotros ya le voy a avisando presentaremos una moción para que no le dé tan igual
si es que quiere escuchar los mandatos de este parlamento nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

eskerrik asko presidente andrea mire señora llanos puede tergiversar mis palabras todo lo que quiera puede reinterpretar mis palabras todo lo que quiera que le he comentado y le he sido

para tratar nada que pueda interferir en las condiciones

de la siguiente contratación conocemos perfectamente las necesidades conocemos qué es lo que funciona bien qué es lo que hay que implementar es necesario modificar ya le he comentado se hacen auditorías internas y externas porque así está además obligado en los pliegos de condiciones por tanto creo que usted estará de acuerdo conmigo en que no procede una reunión previa para hablar de nada que pueda interferir en el establecimiento de unas condiciones en una contratación posterior insisto nuevamente el servicio de atención a las llamadas de urgencia al servicio

y que en euskadi como en otros lugares efectivamente se presta a través de una asistencia contrato de servicios pero la responsabilidad de que el servicio y la adecuada integración en los mecanismos de coordinación de emergencias y de prestación de auxilio siguen siendo un servicio público un servicio integrado en el sistema vasco de emergencias y estamos más que satisfechos del servicio que se está prestando y de cómo se está llevando tanto insisto en aquellos momentos de atención ordinaria como en aquellos momentos de atención extraordinaria y va a seguir siendo así

ya se recogen todas aquellas variantes todas aquellas condiciones que

de que hubiera alguna deficiencia hacer creer a las trabajadoras que hoy están prestando este servicio de una manera profesional insisto de una manera muy profesional

puedan acceder a la función pública de una manera directa sin atender a lo que establece la legislación

pues mire qué quiere que le diga es generar falsas expectativas entendemos que contamos con un servicio bien atendido y que debe seguir siendo gestionado de esta manera lo vamos a hacer una vez más contratándolo con la empresa que más garantías de y lógicamente que cumpla mejor cumpla con los pliegos de condiciones establecidos

la propia ley para estos casos y que al mismo y que al mismo tiempo no cierren la puerta

facilitando los márgenes de gestión necesarios para que las cuestiones de contratación laboral puedan ser abordadas con garantías conforme a derecho tanto

como por parte de la empresa contratante primando a aquellas empresas que mejor planteen la prestación del servicio las cláusulas sociales que legalmente

los planteamientos más adecuados de transición y subrogación y otras cuestiones que redunden lógicamente en beneficio del servicio y también

con esas premisas son con las que estamos trabajando por una parte para que el concurso de licitación se ajuste insisto a los principios

concurrencia e igualdad de oportunidades y evidentemente para que el servicio de atención a las llamadas de emergencia el servicio de atención a las llamadas de siga siendo para todos nosotros y nosotras un servicio de referencia un servicio esencial eficaz eficiente

parte en realidad del sistema vasco de atención a emergencias estamos y seguiremos trabajando en esa línea no

que no conozcamos cuáles son sus situaciones cuáles son sus demandas de carácter laboral y cuáles son

las garantías de prestación de este servicio eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera

y en esa primera intervención usted decía que ese

o por necesidades de jubilaciones y hombre yo querría escucharle que son necesarios por necesidades de seguridad y mi pregunta es por qué

estimación que se dio en la junta de seguridad en el año dos mil cuatro y si desde entonces usted no piensa que han cambiado realmente las circunstancias para ello

el allanar el camino para las promociones veinticinco y veintiséis

que no se ha celebrado esa junta de seguridad sino para corregir un sinsentido el sinsentido de aplicar un criterio de estricto cumplimiento de déficit presupuestario necesidad ineludible de renovación generacional para seguir ofreciendo un servicio de seguridad que la sociedad vasca

ambas que se ajustan a la decisión adoptada por la junta de seguridad fijando en ocho mil el número de agentes necesarios para la ertzaintza beraz arzuaga jauna

van a una reunión de la junta de seguridad con dos puntos en el orden del día uno el incremento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para este territorio porque ese es el marco global en el que han dado esta reunión y segundo para el incremento también a ocho mil de los efectivos de la ertzaintza pues tengo que decir que no comparto no comparto esa decisión comparto con usted que los recursos judiciales que ha presentado el estado

sean correctas y sean razonables y creo que mantener

porque se aceptó ese límite en una reunión de la junta de seguridad en dos mil cuatro no es una decisión ni razonable ni correcta porque en estos catorce años

misma nos dice se ha avanzado se ha mejorado en las tasas de criminalidad se ha mejorado en la percepción de seguridad y yo entiendo

reevaluar esas nuevas necesidades de seguridad para acoplarlas

no se está dando este debate para ello le digo que he registrado hoy mismo una proposición no de ley para que no se haga efectiva esa

que usted nos está anunciando lo hacemos desde un punto de vista de economía desde un punto de vista de evaluar las necesidades de seguridad evaluar los recursos de seguridad solicitando una reducción paulatina también

parámetros pero bueno tendrá ocasión de explicárnoslo insisto y le repito no se ha celebrado junta de seguridad no se ha celebrado junta de seguridad la junta de seguridad

en un número igual por representantes del estado y de la comunidad autónoma nació tres cometidos que hoy aún mantiene fue la junta de seguridad la que pactó el proceso de restauración de los derechos históricos mediante la creación de una nueva policía vasca

también le correspondió y le corresponde ordenar el proceso de transferencia de la competencia aprobando

a ese singular mecanismo que está establecido para la financiación de la

y clarificar el alcance de la distribución de las competencias asumidas y de las que están reservadas

en el que se ha resuelto el proceso de los recursos a las promociones

reclamando exigiendo con determinación determinadas decisiones del gobierno español impulso por el que vamos a seguir trabajando de cara a la

previsiblemente antes del verano para que la coordinación policial entre

para que los recursos asignados por cada una de las partes sean adecuada a las competencias que tenemos asignadas y a las funciones que venimos desarrollando para que todas las decisiones que se adopten también se

institucional y de obligado carácter bilateral este es el camino y este es el camino que hemos recorrido los que hemos creído y creemos
que la ertzaintza es nuestra policía la policía integral de euskadi eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrenda